evolucionando siendo proactiva y anticipándose a las demandas de las y los ciudadanos

la transparencia en la gestión la renovación digital y la rendición de cuentas

públicas y que además pone a su disposición diferentes canales para poder atender a esas demandas que realizan

a la población desde que nos encontramos en situación de pandemia eskerrik asko aldez aurretik eskerrik asko álvarez jauna erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

hemos realizado un considerable esfuerzo reforzando la plantilla de zuzenean personas más para que la atención presencial y la telefónica no se resientan el uso del buzón

también ha aumentado notablemente duplicamos los datos de dos mil diecinueve hemos recibido y respondido

a través de esta plataforma además por mensajería instantánea

cuatro veces más que el año anterior las páginas de la red de portales de euskadieus se han visitado

entre marzo y octubre lo que supone un incremento de catorce millónes con respecto al mismo periodo del año pasado

han generado más de diez millónes de visitas y los contenidos de open data en general

doblando con mucho el total de dos mil diecinueve por su parte la sede electrónica del gobierno vasco

un incremento del noventa y cuatro por ciento por último la opción nire carpeta mi carpeta ha registrado también un significativo crecimiento

usted firma un acuerdo de empleo con la patronal y olvida que existen los sindicatos usted presenta unos proyectos a los fondos europeos y olvida que existen tres territorios

se quedan en la calle cuando se decretó el cierre usted anunció que se mantenían vigentes todos los programas de ayuda para la hostelería el problema

laguntza nahikoak esaten duzue lo digo por tercera o cuarta vez en los últimos días a quién van a creer los trabajadores de la hostelería a usted o a sus cuentas corrientes ezin duzu esan egoera hau aurreikustezina zenik este parlamentario le advirtió al consejero aquí el pasado dieciséis de octubre literalmente qué pasa

la respuesta del gobierno dar largas no prever medidas hablar de nuevos foros interinstitucionales y cuando llega el cierre ninguna medida disponible eta orain inprobisatzen ari zarete

cuando vieron la gigantesca ola movilizadora se olvidaron de eso de estudiaremos si hacen falta más ayudas

esto es complejo de tramitar necesitamos no sé qué estructura interinstitucional

su gobierno se está moviendo solo a remolque de la presión social mediática y política jarraitu zuzentzen eta jarraitu proposatzen dizkizuegun gainerako neurriak hartzen

es imprescindible ofrecer una solución jurídica sólida que permita rebajas en el precio de los alquileres es imprescindible ofertar ayudas estables para el sector

sino que perdura y perdurará siempre que haya restricciones que limiten su actividad

sus necesidades reales de forma integral sin más improvisaciones ni desprecios al sector que articulen en esa mesa un plan integral de rescate a la hostelería

mientras se mantenga la actual situación de crisis está en juego el futuro de la hostelería vasca tal y como la conocemos ya están cerrando cientos de establecimientos y serán muchos más en el futuro los que lo hagan si no se toman medidas esta gente que lleva sufriendo una pesadilla económica física y psicológica

y su gobierno les está fallando necesitan apoyo seguridad protección estabilidad y certezas
respóndales y hágalo ya eskerrik asko casanova jauna lehendakaria

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor casanova ya le he explicado las medidas que hemos venido adoptando desde el pasado veinticuatro de marzo hasta el tres de noviembre
recientemente pasado y que están absolutamente en vigor gauza bat esango

horixe zen zuen proposamena erabateko itxiera eta konfinamendu orokorra no podemos vivir como si el virus no existiera las autoridades sanitarias recomiendan limitar al máximo la interacción y la relación social

dado a conocer hace seis semanas cuando estábamos en el escenario tres ustedes nos han acusado de tener más en cuenta la economía que la vida de las personas acusación rotundamente falsa actuamos desde el principio de responsabilidad y proporcionalidad en las medidas a adoptar en cada momento

que es la salud pública y el mal menor de entre los posibles que son las medidas restrictivas no miremos siempre a otro lado

está en nuestra mano evitar el colapso sanitario y el confinamiento general señor casanova eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

gracias señora presidenta señora vicelehendakari desde su toma de posesión el pasado ocho de septiembre

el reto de favorecer la creación de empleo de calidad como sabe los socialistas valoramos profundamente la importancia del diálogo social

y que se manifiesta también a través de compromiso nítido de este gobierno con la mejor herramienta de concertación con la que contamos que es la mesa de diálogo social

para proteger a los trabajadores y trabajadoras y crear empleo de calidad somos muy conscientes de las distintas visiones que tienen las organizaciones entorno a la mesa de diálogo social

de los distintos sectores empresariales pero más allá de las diferencias que existan en la actualidad nuestro empeño es que allí se sienten todos los que se tienen que sentar porque los socialistas estamos empeñados en la búsqueda de acuerdos y en la concertación

porque desde el diálogo y la negociación es de donde se resuelven los problemas incluso los más enquistados como hemos podido ver recientemente

soluciones en el actual escenario de incertidumbre en el que nos pone la segunda oleada de la pandemia señora vicelehendakari en estos dos meses

desarrollando diferentes reuniones con los agentes sociales que han coincidido

y también con su comparecencia para explicar las líneas estratégicas de su departamento

ronda de contactos nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna erantzuteko

evidentemente en estos dos meses he mantenido más de una veintena de reuniones públicas con todos estos agentes sociales e institucionales y en esas reuniones además de compartir diagnóstico sobre la gravedad de esta crisis hemos querido analizar también

hacer bien porque se han hecho muchas cosas bien desde el gobierno y desde los sectores productivos del país y es lo que explica que en septiembre tuviéramos unos datos del paro esperanzadores y que octubre haya reflejado una intensa recuperación del empleo y de la afiliación

con esa idea antes de que estallara la pandemia habíamos situado el paro por debajo del diez por ciento y antes de que se expandiera la segunda ola habíamos conseguido no solo sostener el empleo amenazado en marzo sino empezar a recuperar el perdido

empleos esto es en dos meses habíamos recuperado el veintisiete por ciento del empleo perdido en los seis meses anteriores las cosas se habían ido enfocando adecuadamente y ahora estamos decididos a combatir la pandemia para poder seguir creciendo crecer

como les suelo decir con innovación con diálogo y con igualdad y en este camino queremos profundizar en el congreso que vamos a celebrar a finales de este mes lo hemos centrado

no solo a los retos de digitalización transición ecológica y transformación demográfica sino también a las oportunidades que se nos presentan en este momento decisivo

una visión transversal del gobierno que cuenta con el resto de las instituciones contamos con la mesa de diálogo social el mejor instrumento de concertación de las políticas públicas

y contamos también con todos los grupos parlamentarios para compartir las medidas que generen oportunidades de empleo de calidad con la formación adecuada a los trabajadores y trabajadoras por eso con las conclusiones del congreso que vamos a celebrar dentro de dos semanas con las líneas estratégicas que ya conocen

sus reflexiones y aportaciones que puedan mejorar esa hoja de ruta porque todos tenemos que ser humildes ante el inmenso reto que nos plantea esta pandemia lo es el gobierno aunque tengamos mayoría absoluta para sacar todos nuestros proyectos adelante

que sabe que no puede ser gobierno pero sí puede demostrar su capacidad de influir en las políticas públicas que este gobierno saque adelante y que marquen el futuro

anteriormente estamos viviendo una profunda crisis de los cuidados por ejemplo sabe conoce la situación a la que se enfrentan las trabajadoras de las residencias ese sector tan tan feminizado

ayer mismo se anunció de hecho en arrasate una huelga y desde luego no es la primera estas situaciones sin embargo se pueden revertir

en esta reunión cuando le entregué el plan duintasunez que proponemos para la construcción de un escudo social vasco y en él proponemos

un pacto vasco por los cuidados y la sostenibilidad de la vida que contemple la creación de un sistema público comunitario de cuidados para propiciar un cambio de modelo con visión de país

cubra las necesidades de nuestra sociedad alcanzando la corresponsabilidad social en los cuidados

la respuesta que obtenemos a este modelo en palabras

es que nuestra propuesta es demagógica y que es social y económicamente insostenible social y económicamente

estamos hablando de cuidado no estamos hablando de un juguete nuevo e innecesario dónde están entonces las coincidencias programáticas si este modelo nuestro que proponemos

la consejera pareció aclararlo con una frase dijo merecería la pena que perdiéramos el cuidado de las familias o la solidaridad organizada de la sociedad civil

es decir un modelo voluntarista que sale gratis a la administración

es sencillamente doloroso es decir quieren que cuidemos gratis y

y la sociedad civil que si seguimos con este modelo

las mujeres cuidarán las mujeres tanto en las familias como

el esfuerzo que se pide a la ciudadanía debe ir acompañado de un esfuerzo de la administración por cubrir los cuidados que no pueden dejar de darse poner las vías en el centro

los trabajos reproductivos y de cuidados que los trabajos productivos no es que un sistema público vasco de cuidados es demagogia sino una obligación

y de justicia social para la con la desigualdad que es

si considero necesario extender un escudo social que proteja a las personas más perjudicadas le he ofrecido todos los datos de lo que es la reorientación del presupuesto como consecuencia

en el caso de la respuesta también por la afección del coronavirus en el seno del labi y también en las relaciones con el gobierno español desde el quince de marzo hasta el veintiséis de octubre

estructuradas en las tres grandes prioridades sanidad cohesión social y recuperación económica y empleo

constatamos la confluencia entre sus propuestas y el programa de gobierno no es tan simple como usted bien decía señora gorrotxategi

lo que usted planteaba de manera muy concreta en la sesión de hoy más allá de lo que era la pregunta formulada al lehendakari y hemos analizado esas propuestas coloreadas en morado según lo que es su propuesta estas propuestos fueron parte de nuestro programa de prioridades

con las entidades y con las instituciones implicadas mire tenemos un presupuesto aprobado y un sistema de protección social que se está demostrando eficaz

nos va a permitir destinar cuatrocientos ochenta y nueve millónes adicionales a salud ciento treinta y ocho millónes a educación o ciento siete millónes a protección social tenemos una disponibilidad presupuestaria en líneas de financiación a través de elkargi

y la disposición a sumar propuestas en este momento tan comprometido

tenemos la oportunidad de dar continuidad a un presupuesto social y eficaz que destina tres de cada cuatro euros a las políticas sociales y protege

reiteramos nuestro ofrecimiento abierto y leal

galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

vacío como están tantos y tantos restaurantes bares y cafeterías en nuestra tierra que no pueden dar cafés cuando usted lo sabe otros establecimientos sí lo dan y hay un agravio comparativo

que da comida para llevar no puede vender un café y tiene que estar buscando las triquiñuelas

yo entiendo que hay que tomar medidas sin duda alguna y que hay que tomar medidas cuando los virólogos además le están pidiendo a usted y a otros presidentes autonómicos que se tienen que tomar esas medidas para luchar contra la covid yo espero que el ínclito

yo he hablado con compañeros que conoce usted y me dicen que es una de las mayores de los mayores

los restaurantes las cafeterías y los bares pero la diferencia es que está en unos en las formas

dando ayudas inmediatamente y ustedes fallaron desde el primer momento el cierre llegó con una falta de anticipación e improvisación por su parte

para bodas y eventos el cierre llegó sin reuniones suficientes con el sector para avisarles

que eran miserias y que son insuficientes como le sigue reclamando el sector

andalucía usted lo sabe ha ofrecido seiscientos sesenta millónes para el sector y euskadi es una de las comunidades más ricas en este país

millónes de euros gastamos en etb millónadas de euros gastamos en cuestiones superfluas millónes y millónes y a los hosteleros a los hosteleros en esta tierra

esto es un derribo a la hostelería que viene sufriendo no desde este mes

que es un sector que ha cumplido a rajatabla con las normas por todo ello

enfadado enrabietado cabreado harto y que le monten manifestaciones para protestar y las montan porque no se ha tomado en serio al sector de la hostelería

usted sabe que ya le han pasado al sector hace dos o tres semanas

los impuestos y que si no pagan esos impuestos luego no van a poder

el sector necesita también que si el cierre es forzoso

autónomos el propio gobierno vasco el sector necesita más ayudas directas como le están pidiendo para alquiler y para hipotecas el sector necesita un plan un plan como se está dando en alemania

donde el setenta y cinco por ciento y usted sabe el setenta y cinco por ciento

en el mes de noviembre del año anterior se le está dando al sector por lo tanto necesitamos sobre todo que el sector tenga garantías para este mes

eskerrik asko legebiltzarburu andrea permítame señor iturgaiz

en los criterios de las autoridades sanitarias atendiendo el análisis de tres factores tasa de incidencia en catorce días índice de reproductividad y porcentaje de ocupación de camas uci que además la estrategia global frente a la covid y sus consecuencias se basa en tres criterios

plan de vigilancia control y rastreo de casos y contactos y plan bizi berri enfocado a la regulación de la actividad y la adaptación de los hábitos sociales

son análisis de las consecuencias de las decisiones adoptadas cercanía escucha y diálogo con el sector y medidas de ayuda con el máximo consenso con los sectores y las instituciones públicas implicadas

el veinticuatro de marzo once días después de la emergencia sanitaria el gobierno vasco puso en marcha las primeras ayudas de urgencia para pequeñas y medianas empresas el treinta y uno de marzo aprobamos el programa de apoyo financiero a profesionales autónomos el diecinueve de mayo un fondo de quince millónes para comercio y hostelería señor iturgaiz lo sabe usted además

propuestos por mí en la primera de las conferencias de presidentes ciento cincuenta euros al mes para quienes tengan ingresos inferiores

diputaciones forales y ayuntamientos han adoptado medidas fiscales de apoyo o de promoción del consumo

este martes hemos ampliado en treinta millónes más las ayudas directas a la hostelería contamos con doscientos cincuenta millónes disponibles de la línea de crédito a empresas y autónomos avalados por elkargi a cero por ciento de interés

de carencia propuesto por el gobierno vasco lo debería saber usted señor iturgaiz hemos comprometido una unidad de gestión urgente con veinte personas dedicadas exclusivamente a acelerar la gestión administrativa de las ayudas a la hostelería todas las instituciones reunidas en el labi

estamos dispuestos a compensar las pérdidas hemos reconocido el esfuerzo

sean lugares seguros y reitero en esta cámara que el sector no es en absoluto culpable de esta situación el comité científico ha entendido necesario adoptar estas medidas porque la evolución de los contagios es creciente es grave y es muy preocupante otras comunidades

es una medida dura pero necesaria para evitar un colapso de nuestro sistema sanitario y garantizar la salud pública

no quería yo entrar en el modelo alemán en este caso señor iturgaiz y no quiero entrar en el modelo alemán

a asumir el modelo alemán del pago del la ayuda del setenta y cinco por ciento de lo facturado en el mes de lo facturado estaríamos dispuestos

señor urkullu que les acusa de no pagar los impuestos que les corresponde a los hosteleros

lo que está usted diciendo yo sí que sé que los hosteleros

buenos días señores señoras parlamentarias consejeros señor lehendakari

deben basarse en un control riguroso y efectivo de las cuestiones básicas que afectan a la materia en cuestión no solo políticas también técnicas más aún cuando nos enfrentamos a una pandemia que está dejando miles de muertos y arruinando a demasiadas familias vascas por todo ello queremos preguntarle

la comisión técnica le aseguro que cuenta con las capacidades necesarias para

más adecuadas cuenta con la experiencia de haber participado desde el día trece de marzo hasta hoy en todas las reuniones de seguimiento diario celebradas para la gestión de la pandemia

señor lehendakari el dilatado pasado de jonan fernández no es el mejor para ofrecerle certidumbre a una sociedad que está sufriendo en carne propia una segunda oleada del covid diecinueve

pues bien es mi intención trasladar algo de memoria a jóvenes y mayores la carrera de jonan fernández comienza en tolosa fue concejal de herri batasuna y portavoz de lurraldea

e hizo el trabajo público de eta para doblegar a las instituciones que querían construir la autovía de leizarán con motivo de la campaña contra la autovía de leizarán

directivo de la empresa ferrovial empresa relacionada con la construcción de la autovía de leizarán el lunes cuatro de marzo del noventa y seis asesinó al ertzaina ramón doral trabaledo y lo hizmo mediante una bomba que había sido colocada bajo su coche

la campaña antiautovía liderada por la coordinadora lurraldea y dirigida por el actual coordenador técnico para la lucha del covid diecinueve jonan fernández

cobrándose la vida de cuatro personas y causando lesiones a otras muchas además de cuantiosas pérdidas económicas

pasó por donde él quiso y por ello tiene una de las pendientes más peligrosas de europa posteriormente fundó

por cierto este salto evolutivo estuvo regado por ayudas públicas superiores a los seis millónes de euros también se les autorizó para financiarse entrar en el mundo de las loterías siempre apostando por el esperpento

donde rebosante de ayudas oficiales puso en marcha baketik donde se dedicó a buscar consenso frente a justicia en abril del dos mil siete es nombrado secretario general de derechos humanos y convivencia

en la actualidad ostenta el cargo de secretario de transición social y agenda dos mil treinta qué puede decir este hombre a koldo cambra responsable del programa de salud de dirección de salud pública a enrique peiró coordinador del programa de salud pública de osakidetza a esteban manuel

subdirector de salud pública en bizkaia o a iñaki gutierrez ibarluzea

qué aportará jonan fernández a este comité técnico que es el encargado de elaborar cada quince días los diagnósticos y las propuestas sobre la lucha contra la pandemia

activista con toda seguridad la dirección política

en lo que sí que es experto un absoluto disparate eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez la comisión técnica del labi desempeña una función clave en la respuesta a la pandemia

sesiones de trabajo la comisión está conformada por las personas que usted ha mencionado y otras más personas especializadas en salud pública en prevención en microbiología y en epidemiología participan también además de las personas que usted ha citado los directores de los centros de investigación de salud planigune y bioef participan en la comisión

así como dos responsables de régimen jurídico el análisis y la propuesta de medidas corresponde a las y los expertos profesionales

de seguimiento de evaluación y de control ya le he explicado cuál es la función de jonan fernández que no es más que la de coordinar esa comisión técnica

además de las biografías que de cada uno de nosotros quiera usted buscar de manera sesgada señora martínez quienes tenemos una responsabilidad pública hemos tenido que sumergirnos en un universo técnico y científico que hasta hace nueve meses nos era desconocido

para mí para usted supongo que también y supongo que para la mayoría de quienes nos encontramos en este parlamento en este momento toda la estructura del gobierno vasco está centrada en ofrecer lo mejor y la mejor respuesta posible a la pandemia esta es la prioridad también

la secretaría de acción exterior por ejemplo chequea y monitoriza mediante informes la evaluación de la situación en el ámbito internacional y las medidas que van adoptando otros países

realiza un seguimiento de las consecuencias de la pandemia y coordina el programa berpiztu de reactivación económica y de empleo la comisionada de ciencia tecnología

está elaborando el nuevo plan en el horizonte dos mil treinta que cuenta entre sus prioridades con la salud personalizada la secretaría de transición social y agenda

entre la comisión técnica y el consejo asesor del labi nuestra obligación es analizar la situación y tomar las decisiones más adecuadas

especializados técnicos y científicos mi compromiso es que todas las personas del gobierno den lo mejor de sí mismas con la mejor voluntad

y así lo están haciendo ofreciendo su capacidad y ofreciendo su experiencia trabajando en equipo y sumando el máximo de aportaciones posibles

todas las energías y capacidades son necesarias y son de utilidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

muchas gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días

pero sobre todo para los habitantes de los municipios más pequeños de nuestra tierra son frecuentes las relaciones sociales económicas

incluso estas relaciones se producen también con municipios de otras comunidades autónomas vecinas se están produciendo dificultades y situaciones muy complicadas por la aplicación de las restricciones de movilidad de la covid diecinueve principalmente en álava

una preocupación de las personas que viven en esos pequeños pueblos en esos pequeños municipios de nuestro país y por eso más que una pregunta esta podría ser una petición o una sugerencia a quien dirige o preside el labi

y las actuaciones para que la vida se desarrolle de la manera más normal posible dentro de esa excepcionalidad y su movilidad sea mayor y mejor las de esos habitantes de los municipios pequeños municipios pequeños de la rioja alavesa de añana cercanos

podrían tener una posibilidad de acceso a esas localidades para realizar sus

administrativo de una manera mucho mejor ahora no se puede como usted bien sabe por eso nosotros le preguntamos si

posibilidad de permitir una mayor y mejor movilidad de los habitantes de los municipios con menor población

servicios y vuelvo a decir fundamentalmente a esos que pertenecen a otras comunidades autónomas vecinas muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio esta posibilidad que usted plantea está contemplada

pueden desplazarse a otro municipio incluso de otra comunidad autónoma el decreto treinta y seis barra dos mil veinte en su artículo dos punto tres

ahora bien recoge las excepciones previstas y permite la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual

incluso deportivas o individuales o de actividad física al aire libre por lo tanto esta posibilidad está contemplada eskerrik asko

señor lehendakari gracias por su contestación están contempladas algunas posibilidades pero no

el acceso normal de las personas en relación con sus necesidades vuelvo a decir

con la alimentación con la farmacia con los cajeros con determinadas situaciones puntuales sanitarias no programadas

en relación con personas de labastida en relación con haro en relación con personas de

o personas de zambrana en relación con miranda es que nos lo han comunicado esa imposibilidad es decir si usted me dice eso y se está produciendo una circunstancia

o algo no está bien coordinado en relación con lo que tiene que ser los accesos en la función policial la función de control con otras comunidades autónomas

que tiene que ser mucho más clara la negociación las cuestiones los criterios que vengan en las órdenes

de actuaciones de normas en relación con este tema está bien claro que hay una preocupación nos lo transmiten todos los días ciudadanas y ciudadanos de todos esos pequeños municipios

porque hay falta de información eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio falta de información no vamos a ver si con mi esta segunda intervención en relación a su pregunta ayudo a hacer una mejor interpretación para todas y todos los ciudadanos que se encuentren en esa situación sean de álava como sean de vizcaya también en vizcaya tenemos situaciones que se dan

comunidades autónomas mire la norma general es la limitación de entrada y salida en cada término municipal o de cada término municipal y esta es la mejor garantía para evitar

y con este objetivo los desplazamientos ordinarios para adquirir alimentos u otros productos necesarios deben realizarse en los establecimientos comerciales ubicados en el término municipal de residencia o en municipios colindantes

se permite el desplazamiento a un centro o establecimiento comercial que se encuentre lo más cerca posible al municipio de residencia servicios y suministros que no se presten en la localidad de residencia o colindante siempre con carácter excepcional si la localidad más cercana

también se podría realizar siempre conforme a las excepciones previstas

por el que se declara el estado de alarma y también en el decreto que firmé como lehendakari las personas que habitan en localidades pequeñas pueden desplazarse a otro municipio que les ofrezca

suministro incluso de otra comunidad autónoma siempre que esta localidad no esté confinada este desplazamiento es posible si responde

motivos sanitarios o veterinarios de urgencia obligaciones laborales profesionales empresariales institucionales o legales retorno al lugar de residencia habitual asistencia y cuidado a personas mayores menores dependientes personas con discapacidad o especialmente vulnerables repostaje

y este desplazamiento encaja con la excepción denominada situación de necesidad está previsto y puede realizarse con carácter excepcional y siempre insisto que la localidad de la otra comunidad no esté confinada en todo caso

la restricción de la movilidad para evitar la transmisión comunitaria del virus

apelo a lo que pueda ser la interpretación correcta del decreto que firmé como lehendakari que he explicado en esta sesión y apelo en todo caso a que todas
y todos actuemos con responsabilidad eskerrik asko eskerrik asko

y más preocupante todavía un veinte por ciento antes de los dieciocho

este fenómeno desde dos mil quince se ha triplicado la inversión en publicidad de los operadores del juego de ciento treinta millónes de euros anuales en dos mil quince a trescientos sesenta y cinco millónes en dos mil veinte y esto pensamos que tiene una relación directa con el incremento de jugadores jóvenes por una parte

según datos del gobierno de españa el segmento de jugadores jóvenes entre dieciocho y veinticinco años en dos mil dieciséis representaba el veintinueve por ciento

por ciento tenemos un serio problema con este tema el gobierno de españa tiene las competencias

la estética y se acaba de aprobar un real decreto de comunicaciones comerciales del juego donde se regula y se limita la publicidad se prohíben las actividades de patrocinio en camisetas nombres de equipos etcétera

relevantes que pueden tener influencia en las personas jóvenes y se prohíben los

salvo la franja de la una a las cinco de la mañana pero es competencia del gobierno vasco la regulación del juego presencial y de la publicidad llamémosla por resumir estática por tanto le pregunto señor erkoreka qué medidas está tomando el gobierno vasco para paliar el aumento del juego entre menores y la juventud en general eskerrik asko

efectivamente como bien señala usted hace unos días se aprobó por parte del gobierno central el real decreto novecientos cincuenta y ocho barra dos mil veinte de tres de noviembre de comunicaciones comerciales

el gobierno vasco ha colaborado ha contribuido a la elaboración de

a través de las aportaciones y alegaciones que hizo durante el proceso de elaboración hizo alegaciones de dos tipos algunas competenciales otras relativas al contenido en general planteando medidas más restrictivas y aunque alguna ha sido tomada en consideración lo cierto es que tampoco se nos ha prestado demasiada atención por parte del gobierno central eso no significa que la norma

era urgente estaba planteada como seguro que usted sabe desde el año dos mil quince

los que han impedido la aprobación en tiempo y forma de la norma no y es necesaria e incluso urgente como decía sobre todo porque viene a dar respuesta a la problemática específica

por lo que respecta al gobierno vasco el departamento de seguridad tiene encomendada la tarea de promover la responsabilidad social

y también la de realizar campañas de concienciación y sensibilización para el juego responsable y con garantías

que se desarrolla en los últimos años está articulada en torno a esta idea en la idea de proteger sobre todo a los colectivos vulnerables que

y en las personas con capacidades diversas esto es así desde hace ya prácticamente una década pero lo es con especial intensidad a partir del año dos mil dieciséis en que se aprobó el reglamento general del juego aquí en euskadi que dedica nada menos que un capítulo entero el décimosegundo en la regulación de esta materia la regulación de la publicidad en el ámbito del juego por tanto es una cuestión nueva esta que apunta el real decreto

la labor del juego la labor del departamento de seguridad no se circunscribe

labores preventivas y de sensibilización actúa también a través de los servicios de inspección de la dirección de juego y espectáculos a través de actuaciones directas

dato que ilustra creo yo la actividad que se desarrolla en este terreno

se practicaron tres mil seiscientos cincuenta inspecciones por parte de la dirección de juego y espectáculos y servicios de inspección y se abrieron nueve expedientes

la labor por tanto se lleva a cabo en el ámbito de la prevención de la concienciación y también en el ámbito operativo sobre el terreno a través de la inspección eskerrik asko eskerrik asko

muchos los conocemos también a través de los propios informes del observatorio vasco del juego un observatorio

que valoramos enormemente pero también es verdad que en la ejecución del presupuesto del año dos mil veinte nos encontramos que el programa de prevención del juego no responsable y el programa de prevención de ludopatía tenía previsto un presupuesto de doscientos treinta mil euros y la ejecución al día de hoy es de quinientos noventa y nueve

el esfuerzo tiene que ser mayor pensamos que hay que ir más allá pensamos y volveremos a presentar por parte de nuestro grupo parlamentario en las próximas en los próximos días la proposición

de euskadi y esperemos que por parte del gobierno vasco haya voluntad de avanzar

y nuestras principales propuestas y pensamos que sería interesante que el gobierno vasco las hiciera suyas sería establecer

autónomas la distancia máxima de las casas de apuestas de quinientos metros

identificar en el sistema la prohibición total de la publicidad en los centros públicos

en los medios de transporte donde además ahora la norma hace especialmente referencia a los menores pero pensamos que además

ampliar y también equiparar al máximo la regulación que podemos hacer en euskadi de la publicidad a

señorías en euskadi como saben prestan sus servicios distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluyendo la policía autonómica la ertzaintza y las policías locales

este parlamentario ya le insistió en la necesidad de aumentar los mecanismos de cooperación y colaboración con las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que ejercen sus competencias también en euskadi particularmente

la declaración del estado de alarma la aprobación de los decretos correspondientes autonómicos para implementar estas medidas en euskadi

distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que prestan sus servicios también en las comunidades limítrofes

primero y coonsejero de seguridad le planteo la siguiente pregunta qué medidas de coordinación tiene previsto desarrollar su departamento con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que prestan sus servicios en la comunidad de euskadi
especialmente en lo que respecta a la policía nacional y la guardia civil muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

supongo que será consciente de que su pregunta tal y como viene formulada

en el formato una pregunta oral en pleno no por lo menos con un mínimo de rigor

lo más sintética posible en euskadi la coordinación policial que quiero insistir ya lo hice en mi primera comparecencia es uno de los grandes postulados del espacio europeo

y seguridad se desarrollan en términos y en marcos diferentes según se trate o según se produzca dentro de la policía

y los ochenta cuerpos de policía local constituidos en el ámbito municipal o tenga lugar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado vaya por delante mi compromiso y mi voluntad inequívoca de mantener y si hace el caso

coordinación policial que vienen funcionando con eficacia en los últimos tiempos

primer ámbito en el ámbito interno de lo que se llama la policía del país vasco la coordinación se produce dentro de las condiciones fijadas por las leyes aprobadas por este mismo parlamento no y se articula a través de diferentes instrumentos comisiones de coordinación policial locales y comarcales

cuerpos policiales municipales a través del uso conjunto de redes de comunicación como tetra reuniones semanales de coordinación operativa en cada demarcación de la ertzaintza etcétera etcétera la segunda cooperación ámbito de cooperación por mandato estatutario tiene que producirse en el marco de la junta de seguridad que ya en reunión de

para operar a nivel más efectivo diferentes niveles y diferentes tipos de comisiones técnicas que hagan efectiva esa coordinación hay una comisión técnica de coordinación operativa

en tres ámbitos investigación criminal y policía judicial en el ámbito de la información y en el ámbito de la protección ciudadana el año dos mil veinte

a lo cotidiano y a la dinámica que generaba la pandemia y a las urgencias sociales

convocadas de manera conjunta por la delegación del gobierno y por la viceconsejería de seguridad de manera que entre marzo y junio tuvieron lugar hasta nueve reuniones

efectivo y rápido ahora con la nueva alarma se reunió el cinco de noviembre pasado para tratar entre otras cuestiones

está funcionando y mi voluntad es mantener este mecanismo de coordinación a todos los niveles eskerrik asko

erkoreka por las explicaciones hombre si quiere más adelante le planteo una interpelación y ya podemos discutir con un poco más

le digo esto porque antes también en la intervención de mi compañero carmelo barrio pues ha puesto sobre la mesa la problemática de que va surgiendo que es normal que es de la cotidianidad cuando se ve afectado el derecho a la libre circulación y las personas que pues a lo mejor viven en una comunidad limítrofe trabajan en euskadi

de tener que tener pues lo que se llaman ahora los certificados salvoconductos laborales para poder circular etcétera etcétera y eso

requiere una serie de pasos y sobre todo requiere una serie de medidas de coordinación administrativa

a cierta colaboración con la policía nacional y la guardia civil por lo menos de cara a la galería luego la verdad es que la realidad siempre ha pasado por encima pero hay algún ayuntamiento en alguna ciudad donde usted y yo vivimos por ejemplo donde hombre hay una cierta reticencia a integrar a la policía nacional y a la guardia civil por ejemplo

lo que le digo simplemente señor erkoreka y le repito que le agradezco su explicación y me congratulo en lo que me dice

no solamente entre las administraciones en general sino con las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular porque por ejemplo el documento que se ha aprobado por parte de su departamento esos criterios de

que es un poco el manual de uso y la respuesta a las preguntas frecuentes que puede tener la ciudadanía yo me pregunto también si eso se ha coordinado con otras policías y otras

porque lo cierto es que en esta situación las administraciones en general estamos mandando un mensaje muy negativo en la ciudadanía de

yo creo que es muy necesario mandar un mensaje tranquilizador pero sobre todo mandar un mensaje en aras a aumentar esa seguridad jurídica y a aumentar esas medidas de coordinación para el bienestar de los ciudadanos porque en esto

para garantizar la seguridad pública y para ofrecer a la ciudadanía

el tema de la coordinación ya le he dicho que es un puntal en el principio del espacio europeo

y estoy absolutamente convencido de que cada uno desde las competencias que tiene legalmente atribuidas

a integrarse y a actuar de manera coordinada en términos distintos como le he dicho según se trate de policía del país vasco propiamente dicha

egiten dizkigutelako porque estamos a punto

sino también el futuro de nuestro pueblo el nuestro parece ser la generación perdida la que se ha quedado sin oportunidades pero sabemos perfectamente que las oportunidades no se pierden sin más que normalmente las oportunidades

nork ordainduko dituen zuen esku dago y sentimos que de alguna manera justificáis la precariedad que se entiende que ser joven y ser precaria van de la mano como si no hubiese ninguna alternativa pero consejera saben ustedes también que hay alternativas y que esas alternativas pasan

sortzen digutenak guri egunero señoras y señores no son solo datos son vivencias y vidas

entre estas cuatro paredes algunos y algunas no quieren hablar de lo real de lo que la gente vive en sus propias carnes prekarietatera kondenatu duzuen gazte

ere ez dutela o de todas esas personas que sin papeles ni derechos se han quedado en la calle sin nada

y nadie los ve y parece que aquí lo que no se ve no existe estas personas no tienen nada

la realidad agobia verdad pues imagínense vivirla qué tiene que ser eta horregatik eta benetan diot aurretik ere beste momenturen batean galdetu izan duguna

y sabemos cómo sigue la canción un error un error

cuál es nuestra guía de actuación garantizar la salud de todas las personas reactivar la economía y el empleo y no dejar a nadie atrás

ni a ningún otro colectivo con especiales dificultades y se lo dije el día de mi comparecencia y se lo quiero repetir hoy aquí este gobierno tiene una alternativa al desempleo juvenil a la precariedad que les afecta y a los problemas específicos a los que se enfrentan los jóvenes para poder tener una vida independiente y digna

es un error confrontar las necesidades de las personas jóvenes con las necesidades de formación y confrontarlas con las necesidades que tienen los mayores de cuarenta y cinco años

y una cosa importante los jóvenes pueden tener una gran formación pero también necesitan perfilar bien esa formación para ajustarla a las necesidades de las empresas hoy en día pero déjeme además hacerle un diagnóstico aproximado de dónde estamos y a dónde queremos llegar la fotografía de hoy la que nos ofrecen los últimos datos consolidados con los que contamos que son los referidos al mes de octubre

ni triunfalismos ni catastrofismos tampoco exclusivamente el realismo porque a veces una fotografía nos puede distorsionar la realidad

el mismo mes de otros años podríamos calificarlos de buenos lo serían en general con el mayor descenso del paro en dos décadas pero lo sería en particular entre los jóvenes

un cincuenta y cinco por ciento en el último año pero con ese principio de realismo que le decía a pesar de todo esto le digo tenemos un serio problema como usted apuntaba tenemos

de cuarenta y cinco años en idéntica situación los primeros en muchos casos ni siquiera han tenido una primera oportunidad para tener un empleo y los segundos en su mayor parte llevan demasiado tiempo en el desempleo y no encuentran un trabajo con el que continuar estando activos porque le quiero añadir otro dato ya para completar el cuadro el paro de larga duración ha aumentado

en el último año y son ya el cincuenta y uno por ciento de los desempleados

que siguen esperando un trabajo pero también sabemos que las personas más afectadas por el mercado laboral han sido las que están en una situación más vulnerable las que entran y salen constantemente de los empleos por eso en septiembre aumentó de forma significativa el paro de corta duración el mes pasado y en octubre

donde encontramos en gran medida a los jóvenes le he querido hacer esta descripción completa del mercado laboral para que seamos capaces de entender una situación que es extraordinariamente compleja una situación en la que este departamento ya le he dicho no va a dejar a nadie atrás

está hoy preguntando y a nuestro gobierno también le preocupa porque nos proyectan al futuro al empleo que queremos en la sociedad que queremos ser en progreso

por eso nuestras intenciones son claras nuestro primer eje de actuación nuestra prioridad es el empleo nuestro primer compromiso era aprobar un programa marco para la reactivación económica y del empleo y lo aprobamos a las dos semanas de empezar a andar es la estrategia berpiztu estrategia que hemos compartido y enriquecido

porque usted también lo recordará lo primero que hice en cuanto llegué al departamento fue llamarles a todos sin distinción y todos me han trasladado propuestas sobre las que ya trabaja el departamento pero le hablaba solo de la primera de las actuaciones del gobierno y le sigo con el segundo de los compromisos aprobar un plan de empleo alineado

la iniciativa cuatro de todo el programa plan de choque de empleo juvenil para qué pues para facilitar una primera experiencia laboral a veinte mil jóvenes este plan

los siguientes la formación dual para el empleo juvenil la transición del mundo educativo al laboral becas de formación y experiencia profesional con compromiso de contratación programas específicos para la inserción y el empleo juvenil desarrollo del emprendimiento el autoempleo

ofertas de empleo público y programas para reducir la precariedad en el empleo especialmente en el colectivo juvenil no es una declaración de intenciones porque está tasado específicamente ciento sesenta y dos millónes de euros de inversión para esta legislatura

estrategia de emancipación juvenil es una estrategia interdepartamental que lidera el departamento de igualdad justicia y políticas sociales pero que nosotros como departamento de trabajo y empleo tenemos una actuación específica para garantizar ese proceso de emancipación

una ley innovadora estratégica e integral para los jóvenes y entonces esto que usted me plantea

porque el acceso al empleo y la calidad del mismo es esencial para que las personas jóvenes puedan acceder a una vida y este parlamento entonces no consideró necesaria esa regulación pero hoy vuelve a estar en nuestra agenda y espero que cuando venga a esta cámara todos tengamos

y sigo con las medidas sobre la precariedad entre la juventud hace un mes su grupo me realizó una interpelación similar a la suya pero hablando en general del empleo y la calidad en el empleo yo ahí les di cuenta de un decálogo sobre todos los instrumentos que hacen posible el empleo de calidad que es perfectamente aplicable a los jóvenes hace escasamente ocho días este parlamento aprobó una proposición no de ley sobre esta cuestión por tanto

a qué principios que a principios del próximo año perdón después de culminada la tramitación y la aprobación de los presupuestos aprobaremos la estrategia vasca de empleo trabajando en esa estrategia y como me habrá escuchado en la pregunta anterior queremos contar con todos los grupos también con el suyo queremos recibir sus aportaciones y sus ideas

una guía de país para todas las instituciones para todos los agentes que intervienen en la creación de empleo y también para las personas jóvenes pero ni siquiera eso será la única vía

orientación e intermediación para los jóvenes soy plenamente consciente de que a la juventud le afectan especialmente las condiciones de trabajo y los bajos salarios cuestiones que como usted sabe exceden a la intervención de este gobierno vasco

que yo hoy les he hablado de cómo cuento con su implicación para que acordemos las políticas de empleo que están en nuestra mano en la mano del gobierno vasco pero también les apelo a que se impliquen

pienso por ejemplo en el nuevo estatuto de los trabajadores que necesitan todas las personas trabajadoras un estatuto para el siglo veintiuno que compagine las necesidades de las empresas con la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos a los que nos enfrentamos con la transición ecológica y sociosanitaria pienso también en la importancia de la negociación colectiva

permite desatascar conflictos e implicar a todos los agentes sociales y aquí su formación no solo el gobierno tiene también mucha tarea podemos generar ocasiones para el empleo juvenil pero solo conseguiremos que sea de calidad si conseguimos implicar a todos los agentes sociales institucionales y políticos esta es una tarea del gobierno pero también de la oposición eskerrik asko

cuando entré yo aquí me hablaban un montón de planes de choque planes de choque de empleo juvenil y yo decía pero qué será exactamente eso porque yo no entendía muy bien en qué se basaban

qué es un plan de choque del empleo juvenil y es exactamente eso un plan un plan que dice que tenemos que hacer un plan pues básicamente como mis planes para dos mil veinte que no se ha cumplido ni uno porque la coyuntura no lo dejaba

en la página nueve en donde se explican los compromisos que hay que crear veinticinco mil experiencias laborales primeras experiencias laborales para el empleo juvenil y luego en la página cincuenta y siete eso aumenta esa cifra aumenta a treinta mil y décimos pero qué ha pasado con esos cinco mil o sea

es que digo más es que no se están creando puestos de empleo es que se están destruyendo día a día y no sé que entiendo que fallos tenemos todos y todos somos humanos

sois vosotros es este gobierno y creo que nos tenemos que centrar un poquito porque no vemos ninguna diferencia y al no ver diferencia pues

eskerrik asko yo entiendo son tiempos de incertidumbre para todos

para los gobiernos para todos para los jóvenes para los mayores estamos rodeados de incertidumbre y tenemos que saber navegar estas aguas llenas de incertidumbres es el tiempo que nos ha tocado

y en esto tenemos que ser capaces de trabajar y yo entiendo el desasosiego que eso puede generar en la juventud mucho desasosiego porque no ves un horizonte claro

pero fundamentalmente creo que tenemos dos ingredientes importantes para navegar estos tiempos de incertidumbre que permiten mantener el timón firme de la nave uno es la estabilidad la estabilidad política es

para generar un clima de sosiego y tranquilidad donde se puedan generar oportunidades de empleo que es creo el objetivo de todos los que nos sentamos en esta cámara otro ingrediente importante que es tener todas las instituciones alineadas con un objetivo común con unos objetivos comunes y en ese sentido

en las reuniones que he mantenido con las instituciones además de con los agentes sociales he encontrado que compartimos los objetivos y que hay voluntad de trabajar conjuntamente creo que eso es

sobre el tema del empleo y yo decirle que tengo un mandato de este parlamento que se aprobó la semana pasada y que se aprobó por el conjunto de la cámara salvo por su grupo y por el mixto vox

de calidad como eje prioritario del gobierno

económicos y sociales y usted decía y los jóvenes dónde están hombre yo entiendo que los jóvenes como usted militan en partidos políticos participan en plataformas políticas

hacen llegar a los gobiernos a las instituciones las demandas que están sintiendo pero en concreto cuando la consejera de igualdad ponga en marcha

también evidentemente tomará parte el consejo de la juventud

todos los agentes son importantes y no queremos que ningún agente se descuelgue del compromiso que es buscar una salida justa a esta crisis y no dejar a nadie atrás por eso les implicamos y queremos seguir implicándoles a todos en el programa y lo vamos a hacer también con lo que le comentaba que es la estrategia de empleo dos mil treinta y en esa estrategia de país

en todas las instituciones vascas y todo eso es fundamental para mejorar la calidad del empleo juvenil pero además vamos a cumplir el compromiso expreso

tan poca garantía le ofrece pero que va a ser un plan para dar oportunidad de empleo a los jóvenes y hay una cosa añadida que antes he anunciado y es que me voy a reunir con todos los grupos y yo creo que ahí tenemos una oportunidad todos los grupos de la cámara de hacer aportaciones para

en los planes posteriores lo que hacemos en política en estas cuatro paredes como usted decía en su intervención yo creo que todos los que vivimos aquí los que nos sentamos en esta cámara vivimos la realidad de la vida tenemos familia tenemos amigos tenemos personas conocidas en el desempleo

mujeres solas con hijos a su cargo yo tengo hijos jóvenes

para encontrar un empleo y yo lo que quiero es que trabajemos juntos por poner en marcha las mejores políticas públicas en favor del empleo de los jóvenes y aquí

y nosotros nos vamos a encontrar si estamos por el camino de construir unas mejores condiciones de empleo que mejoren la vida de todos y donde no nos encontraremos desde luego es derribando ningún régimen como dijo ayer su compañero de bancada eskerrik asko

legebiltzarkideok tapia sailburua egun on el desperdicio de alimentos es uno de los asuntos más sangrantes bueno uno de los más sangrantes que tenemos encima de la mesa y en nuestros contenedores de basura ha sido tratado en este parlamento a lo largo de los años pero parece que no hemos avanzado

y a día de hoy se siguen tirando cientos y cientos de kilos de comida en buen estado a la basura incluso en este parlamento se han aprobado varias proposiciones

en dos mil dieciséis la ley vasca para evitar el desperdicio de alimentos y en dos mil diecisiete para evaluar las medidas adoptadas por el gobierno para reducir dichos desperdicios

en los momentos que estamos viviendo con las imágenes de la primera ola de la pandemia

en los comedores sociales o haciendo cola para recoger

estamos ya en la segunda ola vemos que cada vez la situación se pone peor vemos que hay muchos niños y niñas que no tienen cubierto su derecho a una alimentación suficiente en calidad y en cantidad cuando se nos apela continuamente a la responsabilidad personal pero la sociedad nos pide responsabilidad política les pide como gobierno que son ejercer esa responsabilidad

elaborada y pagada con dinero público y no se tomen medidas concretas y efectivas para evitarlo los datos que aportaba elika decían que

desperdicia que viene de la hostelería restauración y catering

que qué pasaba que no entendíamos qué estaba pasando nos decían que no tenían competencias tenemos una respuesta de dos mil dieciséis en que decían que no tienen competencia en la mayoría de las fases de la cadena alimentaria en la producción

y en la restauración en la gestión manipulación y almacenamiento de alimentos

no entendemos porque la mayoría de las empresas de catering trabajen en la restauración

son licitaciones que se hacen desde lo público desde el gobierno vasco es coherente además de justo que desde el gobierno exijan a otros por ejemplo campañas

pero no se apliquen a sí mismos la obligación de reducirlo y es que la cantidad de alimentos que terminan en la basura

es difícilmente excusable por todo ello le preguntamos señora consejera qué medidas concretas y prácticas están implementando a día de hoy para que la restauración colectiva reduzca

pueda llegar a colectivos y personas en situación de vulnerabilidad

egin behar da y hablamos de alimentos y hablamos de una gestión eficiente de los mismos de los recursos que tenemos y tenemos que hablar de que son

que tenemos que cuidar de forma especial desde dos mil dieciocho a principios de dos mil dieciocho desde elika comenzamos a trabajar la estrategia vasca contra el desperdicio alimentario despilfarro alimentario con un doble contenido

decir reducir a la mitad el desperdicio alimentario por habitante

y en el consumo doméstico y por otra parte reducir la pérdida de alimentos en toda la cadena de producción y de distribución de acuerdo con

economía circular se establecieron una serie de actuaciones

de euskadi con sesenta agentes contra el despilfarro de alimentos y tenemos entre esos agentes tanto públicos como privados diferentes en la cadena alimentaria y además organizaciones sociales se abordan seis líneas de actuación como sin duda usted conoce y

realizando pero no se ha finalizado sí observamos que la mayor parte del despilfarro se produce en los hogares más del cincuenta por ciento

se llega un doce por ciento por tanto tenemos que realizar campañas de sensibilización pero más allá tenemos en marcha una guía orientativa que permita la donación de excedentes alimentarios de la restauración colectiva en general a establecimientos autorizados por las autoridades competentes en las condiciones de higiene y de cumplimiento de la legislación

pero segura de esos excedentes alimentarios trabajando además

es una guía que está consensuada y trabajada con salud pública con el gobierno vasco y diferentes ayuntamientos de municipios grandes en concreto con las capitales inicialmente y

la verdad es que tiene razón es que esta pregunta podía ir dirigida también

realmente es que es una pregunta para todos los departamentos yo creo que es un tema que se tienen que poner a trabajarlo interdepartamentalmente porque la sociedad no entiende

hoy en día todavía se sigan tirando alimentos es verdad

eso en términos medioambientales en términos de su departamento son trescientos cuatro millónes de toneladas de ce o dos el seis por ciento de las emisiones de gases

desde euskadi entonces algo tendrán que ver hay que modificar la orden esa orden de sanidad

ya sé que no es de su departamento pero sí del otro esa orden hay que modificarla porque no se puede tener
a niños y niñas con hambre y no pudiendo reutilizar eskerrik asko gonzález andrea amaitu

en una iniciativa denominada jakioro un plato solidario de caserío tratando de utilizar todos los excedentes que existían en aquel momento

para aquellas personas más necesitadas basada

y que nos permite testar pues todo eso que aparece en esa guía

segunda ola además lo que se está observando es que esa guía está resultando
y que en centros educativos de euskadi y en otro tipo de alimentación se está utilizando y el despilfarro es mínimo en estos momentos eskerrik asko tapia andrea

datuak zuen datuak dira nosotros hemos trabajado con los datos referidos a la ejecución presupuestaria que aparecen

financiera pública del gobierno vasco resulta difícil entender que no se reconozcan sus propios datos señor azpiazu a día de hoy si se entra en la página cualquier ciudadano

y si son fake son suyos es verdad que puede haber más datos y es verdad que también esos datos se pueden interpretar con otros criterios desde luego de hecho usted mismo en ese hilo de tuits que realizó para responder a nuestra valoración utilizó tres criterios diferentes habló de gasto consolidado en el caso de salud y osakidetza el del gasto previsto a diciembre en el caso de educación

el esfuerzo presupuestario realizado en otros departamentos que nosotros no vamos a poner en duda pero que no se refieren al programa y en función a eso usted ofrece

como por ejemplo cómo es posible que el gasto extra sanitario

de lunes a viernes se hubiera reducido un cincuenta por ciento porque

anunció trescientos cuarenta millónes que eran millónes extra a la tarde en boca de la

ciento noventa y cinco millónes también nos preguntamos si ese fondo covid del gobierno de españa va a reforzar el gasto de salud o de educación porque

no lo parece no lo recibe y como no nos da el dato de previsión de gasto de salud eso nos hace pensar que el presupuesto

con otras inversiones y luego está el tema del fondo covid

se llegaron a prometer quinientos se han invertido ciento cincuenta pero vamos necesidades

tartean por ejemplo y se hacía eco el deia del gasto

de complemento de los erte se previeron cuarenta mil beneficiarios

menudo escudo porque además esas seis mil personas todavía no han cobrado esa prestación

en una crisis sin precedentes han optado por el equilibrio presupuestario nos dicen que van a poner todos los recursos que sean necesarios que nos endeudaremos pero por lo que vemos se opta por el reajuste de partidas

lotzeko eta behar diren argitasunak emateko gustu handiz gainera le adelanto además que leída la justificación de su interpelación

hasta ligeras coincidencias en el diagnóstico de la situación de urgencia de las medidas económicas a tomar

pero lamentablemente tenemos una lectura distinta del análisis de los datos oficiales sobre ejecución presupuestaria y sobre la utilización de todos los recursos al alcance de este ejecutivo

en mi opinión no solo se han usado los recursos necesarios

proporcionada y transparente sin que la pandemia haya retorcido ninguno de los cimientos del presupuesto de dos mil veinte que ya el momento de su aprobación era eminentemente de corte social ocho de cada diez euros por lo que

sí coincido con usted en que la situación ha requerido incrementar las inversiones y el gasto corriente en sectores como la sanidad o como la educación

y principalmente en la protección de los sectores más afectados pues bien en eso precisamente lo que el gobierno ha hecho y que ahora le echa usted en cara incrementar el gasto y la inversión en esas políticas

estas políticas todos los medios de los que el gobierno ha dispuesto niego rotundamente la mayor

puestas en marcha por esta administración en los últimos siete meses puede asegurar que no se han utilizado los recursos al alcance del gobierno vasco

también el resto de administraciones del arco institucional vasco como son las diputaciones y ayuntamientos los cuales en el uso de sus competencias y posibilidades han demostrado

y de otras instancias para con mayor o menor intensidad arrimar el hombro en los ayuntamientos incluyo a los gestionados por grupo político lógicamente

mucha energía en hacer un recordatorio exhaustivo de las actuaciones

desplegadas por el gobierno o sus diversos departamentos desde el mes de marzo pasado hasta ahora sí quiero aunque sea de manera enunciativa citar aquellos que creo que

así antes que nada quiero poner en valor tanto el foro en sí mismo como el contenido de aquellos acuerdos de la comisión mixta de concierto económico que a través de varios momentos

de nuestras capacidades económicas principalmente en materias de deuda pública pero no solo para las administraciones vascas con las que afrontar los gastos extraordinarios

digo esto porque no son cuestiones ni acuerdos estéticos

o incumplibles sino llenos de contenido político difíciles de negociar y que han allanado el camino para tener un año sin recortes en los gastos

y de gasto corriente para hacer frente a la situación extraordinaria

es lo que de hecho llevamos haciendo desde marzo con iniciativas normativas y presupuestarias sin dejar de atender las necesidades pero con la racionalidad de vida en materia sanitaria por ejemplo hemos dedicado recursos extraordinarios al suministro

tanto en los centros hospitalarios como en la atención asistencial domiciliaria

telefónico se han concertado acuerdos para prestar servicios a través de centros sanitarios privados entre otras muchas actuaciones demostrando la capacidad de reacción del sistema vasco de salud en materia educativa señora kortajarena se ha suspendido el cobro de las cuotas

a las familias así como el cobro de las cuotas de comedor y transporte pero sin embargo se han mantenido las becas de comedor para el alumnado en situación desfavorecida se ha invertido en equipamiento informático

de cara al inicio del curso hemos invertido en equipamientos y suministros de prevención para los centros en obras de acondicionamiento con gastos extra en limpieza y desinfección también se han adoptado medidas para las personas y las familias

de euros la dotación de ayuda económica a las ayudas de emergencia social

y de los gastos de comunidad en el parque público de viviendas y dedicado importantes recursos a las

como consecuencia de la crisis también se han adoptado medidas económicas para empresas y personas autónomas por ejemplo las puestas en marcha del programa bideratu

el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera o el sector del agroturismo

desde el departamento de hacienda mismo hemos puesto en marcha una línea de financiación a través de elkargi dotada con mil millónes de euros y se activó de forma inmediata también

en el ámbito de la actividad turística y comercio y la hostelería además de las ayudas aprobadas en mayo por un importe de quince millónes

esta misma semana se ha aprobado un plan urgente de ayudas directas a la hostelería con una dotación de otros treinta millónes de euros

a las demandas de un sector como el de la hostelería que ha resultado muy afectado por las nuevas medidas sanitarias medidas que quiero dejar claro pretenden evitar la propagación del virus y preservar la salud de las personas

se pretenda culpabilizar o criminalizar al sector como el propio lehendakari ha señalado esta mañana y podría seguir enumerando otro gran número de medidas adoptadas

y al parón de la actividad económica que ha traído consigo horretarako beharrezkoak diren eta lor ditzakegun baliabide guztiak erabili ditugu eta

sí me ha parecido curioso que no quiera hoy enredarse en los datos

que mejor lo hacemos por twitter pero sí que

el motivo de la iniciativa de hoy era analizar el esfuerzo presupuestario para medir con ello

usted hablaba de la prontitud con la que han respondido a la situación de los hosteleros jo la prontitud no sé pregúnteselo a ellos

pues actúo pero mientras tanto cierro la hostelería y luego ya si eso

si el enfado llega a unos puntos pues bastante evidentes

el enfado y el desasosiego de gran parte de la población

en contra de lo que nos dicen con respecto a otras gero esan mobilizazioek ez dutela balio ezertarako herri honetan horrelako gobernu reaktiboekin

entiendo señora kortajarena la controversia generada la pasada semana en redes sociales que haya podido causarle a usted alguna molestia pero no es la primera vez

pero sí le pido rigor en los datos efectivamente los datos que usted utilizó son los que como decían hemos enviado a esta cámara pero no todos y además debemos analizar las cosas como en términos homogéneos para que efectivamente saquemos buenas conclusiones por lo demás con los datos

interesada y poco afortunada en los momentos en los que vivimos contratos incompletos o desenfocados no confundamos

más a la realidad que es la que debemos transmitir a la ciudadanía desde la política y termino con un resumen bastante escueto de lo que este gobierno tiene presupuestado como gastos para el covid

con trescientos millónes de euros a los que habría que añadir otros quinientos millónes en la línea de financiación

hoy con los datos actuales le puedo decir que este programa se encuentra presupuestado

millónes de euros a los que hay que añadir otros gastos que se están cubriendo desde los propios departamentos al margen de estrictamente lo que se denomina programa covid y en total dedicando a solventar los problemas del covid en torno a novecientos cuarenta millónes de euros de momento y cuando tengamos evidentemente

sin ninguna duda es decir también además existen todavía sin utilizar diríamos

para que entre otros los hosteleros acudan a esta línea de financiación

de euros destinados a paliar los efectos de la pandemia que sin duda nos está marcando la pandemia a todos y a todas cuando cerremos las cuentas sabremos con mayor exactitud qué recursos hemos destinado a paliar el efecto del covid

que lo pondremos en su conocimiento señora kortajarena debatamos sobre números y políticas necesarias para afrontar debidamente la situación sanitaria y económica

la pandemia y la crisis económica no van a desaparecer de la noche a la mañana desgraciadamente o sea que tenemos desgraciadamente insisto

de estas cuestiones necesitamos ideas y esfuerzo de todos para hacer mejor las cosas le estoy proponiendo que hablemos del presupuesto y pongamos sobre la mesa proyectos y recursos nosotros lo haremos así podremos analizar los esfuerzos que el gobierno va a realizar a través del presupuesto del año que viene para también los temas

pero me temo para el año que viene también señora kortajarena este año lo estamos digo en el presupuesto para el año que viene también

en esta cámara entrarán los presupuestos a mediados de diciembre dependerá

esto no pasa absolutamente nada no hay que asustar por la falta de presupuestos de un mes

y sus tramitaciones señora presidenta pero quiero insistirles en que cuanto antes lo hagan mejor

me gustaría de verdad que su actitud y compromiso frente a la ciudadanía de euskadi señora kortajarena en estos momentos difíciles como nos encontramos sean como los que ha mostrado con la ciudadanía española o navarra aprobando sus presupuestos
por el señor sánchez y la señora chivite eskerrik asko eskerrik asko

el proyecto bolueta es un proyecto que impulsa vivienda social promovida por las administraciones y

pública tanto vpo como viviendas sociales el cien por ciento de los vecinos ha reclamado la subsanación de los problemas y deficiencias y carencias desde hace ya más de dos años solicitamos al señor consejero de vivienda respuesta a la siguiente pregunta qué medidas van a tomar desde el departamento de vivienda para solucionar los graves problemas que sufren en sus viviendas los vecinos de las torres bolueta promovidas por la promotora

gracias señora presidenta señora larrea las quejas de algunos vecinos de las torres de vivesa en bolueta por el excesivo calentamiento de los pisos

por escrito son

las temperaturas anormalmente altas del verano el calor intenso que se genera por el uso y las características de aislamiento y hermeticidad del edificio que por otra parte garantizan un consumo energético nulo o casi nulo las que dan lugar a esta situación

visesa ha atendido desde el primer momento estas quejas ha investigado las causas

los vecinos de las viviendas de bolueta a los que no se les ha regalado nada se sienten estafados han llegado a invertir hasta ciento ochenta mil euros en unas viviendas

sus hipotecas están viviendo un verdadero infierno y nunca mejor dicho sufren temperaturas superiores a los veinticinco grados durante los meses de abril a septiembre

viviendas que han adquirido aparte de tener un grave problema de climatización y ventilación tienen pequeños fallos tales como grietas fallos en las puertas

solucionados por la promotora visesa empresa pública del gobierno vasco hombre

fallas las pequeñas deficiencias y con respecto a la climatización les dan un curso para enseñarles

dejando los estores abiertos permitiendo que la luz entre por sus ventanas agravando

en los meses de verano pero vamos a explicar realmente lo que nos parece sangrante a nosotros

que por ser el edificio incluso son el edificio más grande en tener

este galardón o este premio esta designación y aquí está el problema

ustedes no están trabajando para los ciudadanos sino para mayor gloria de su gobierno en invierno

las mediciones de temperaturas tan altas y claro debido a una orientación al cúmulo del calor expuesto por las personas dentro de las viviendas

porque sufren temperaturas altísimas una media de veinticinco grados una media de veintiocho grados no bajando de los veinticinco grados a lo largo de todo el día durante tantos meses al final imposibilita el descanso

y yo no soy quién para dar solución a ese edificio porque no tengo estudios de arquitectura pero le diré

a la promotora o a quien haya impulsado esas viviendas sin embargo la colocación de persianas

sostenible ecológicamente pero sí que mejoraría sus circunstancias de vida también les voy a decir que todavía hay en proyección

problemas estos nuevos inquilinos de esas viviendas claro es que ustedes tienen que dar un plazo para solucionar este tipo de problemas porque además estamos hablando

para explicarles cómo tienen que ventilar su casa por la noche hombre

abro la ventana a la hora que sea pero es que no pueden hacerlo en esas viviendas no pueden hacerlo

y ustedes tienen un informe el departamento de planificación vivienda y transporte pidió un informe para saber si ese tipo
de viviendas o ese tipo de climatización era adecuada para eskerrik asko larrea andrea denbora amaitu zaizu arriola jauna zurea da hitza

el noventa y dos por ciento de las incidencias comunicadas en las dos torres las habituales

han sido ya resueltas por visesa hay que indicar que en casi todos los pisos

en los meses más cálidos una sensación que se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del cambio climático que está trayendo temperaturas extremas como los treinta y ocho coma nueve grados registrados en bilbao

para paliar el calentamiento las viviendas tienen como opción

es cierto que estas alternativas son más problemáticas en los edificios más modernos como el de bolueta

de hecho tenemos conocimiento de que esta casuística se está dando también

tanto públicas como privadas lo que sucede es que estas situaciones no se han traducido en quejas en los medios de comunicación pero es una realidad

desde la normativa técnica de edificación porque vamos a tener que adaptarnos al calentamiento de la atmósfera qué se ha hecho para atender las quejas de bolueta

entre los meses de marzo y septiembre visesa ha monitorizado el comportamiento energético

se han controlado en continuo la temperatura humedad y calidad del aire interior y se han hecho simulaciones en paralelo a lo largo del verano se han realizado once sesiones con asistencia de ciento treinta y ocho personas

con el fin de mejorar el confort térmico precisamente porque son viviendas passivhaus para que la gente conozca realmente lo que tiene que hacer

y monitorización específica de otras diez viviendas voluntarias y un canal de atención abierto a todas las personas residentes y aunque el estudio no ha concluido ya hay algunos datos preliminares que el edificio cumple con la motiva relativa al confort térmico y

en cuanto al diseño y ejecución de la obra que el consumo de calefacción es prácticamente nulo

este hecho unido a la insolación como le comentaba de algunos pisos por su orientación es la causa más evidente de las temperaturas alcanzadas y para dar respuesta a esta situación como le he dicho en mi primera intervención se está analizando por parte de visesa posibles alternativas técnicas que se pondrán a disposición de los vecinos

me voy a detener un minuto en hacer una somera foto de nuestro día a día

nos saludamos tocándonos los codos limitación de visitas en residencias de mayores en hospitales las reuniones no pueden ser de más de seis personas ni siquiera en nuestros hogares

toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la mañana no se puede comprar alcohol en un supermercado pasadas las ocho de la tarde cierre perimetral de municipios y de la comunidad

así estamos ahora pero hace bien poco estábamos de otra forma diferente de hecho no hace mucho las mascarillas no eran obligatorias

podíamos viajar entre municipios sin salir de nuestra comunidad autónoma

podíamos salir de casa a las once de la noche soy consciente de que estamos inmersos en una pandemia cambiante que obliga a adecuar medidas y a tomar decisiones cada poco tiempo

y según sus propias declaraciones todas y cada una de las medidas estaban avaladas por criterios científicos eran consecuencia de informes elaborados por expertos aquellos que asesoran a este gobierno pero no hemos visto un solo informe

nada más allá de esa genérica necesidad de limitar movimientos y minimizar el contacto social en la calle nos preguntamos por qué la covid diecinueve es tan contagiosa en bares y restaurantes incluso en terrazas y no lo es en metro

donde además se concentran decenas de padres madres y alumnos

mientras que en cataluña van a peor con persianas cerradas y terrazas vacías no pongo en duda que los miembros del comité de vigilancia y control de casos estén trabajando a destajo que también lo estén haciendo los integrantes del comité técnico de la covid diecinueve y de labi

qué debaten manejan ustedes informes coincidentes o han de elegir entre diferentes opciones porque me consta que hay muchas discrepancias entre expertos

economistas juristas esto es lo lógico es lo normal los expertos emiten informes técnicos y el político toma decisiones acertadas o no la sabiduría obviamente es de los técnicos la responsabilidad de las decisiones de los políticos pero el señor sánchez pedro sánchez sentó un peligroso precedente

de ahí que sea muy importante que usted que el lehendakari hagan públicos esos informes que soportan sus decisiones para que la ciudadanía sepa y entienda

sepan porqué sus negocios están agonizando con las luces apagadas y las persianas bajadas para que las parejas separadas por dos municipios

es más su resistencia a hacerlos públicos pone en tela de juicio su propia existencia y nos hace sospechar que las decisiones sean exclusivamente políticas de principio a fin en el proceso intervienen muchas personas cuyo conocimiento técnico no voy a poner en duda pero es un hecho que la inmensa mayoría de ellas ocupan cargos de designación política consejeros viceconsejeros directores subdirectores

cargos que conllevan una notable dependencia de quien les ha nombrado esto es así aunque intenten trucar la fotografía y esto lo condiciona todo también los resultados en este momento la oportunidad política o el impacto de las medidas en términos electorales

quiero imaginar que expertos de diferentes ámbitos presentan informes coincidentes o no quiero imaginar que estos informes se discuten

que se presentan propuestas de acuerdo y que se adoptan decisiones meditadas valoradas y sopesadas pero cuáles son los criterios que se tienen en cuenta son políticos son sanitarios un cuarenta sesenta un setenta y cinco veinticinco

ni a nosotros ni a los ciudadanos padres y madres empresarios autónomos trabajadores desempleados funcionarios periodistas que quieren saber que queremos saber que necesitamos certidumbres

los criterios científicos que supuestamente guían sus actuaciones y avalan sus decisiones acabarían con la impresión muy extendida en las calles de que carecen de la más mínima capacidad de prevenir que están improvisando permanentemente condenando a la ruina a miles y miles de familias

avaló que era asegura la convocatoria de elecciones el doce de julio me encantaría conocer el informe que desaconsejó contratar y formar a suficientes rastreadores en euskadi

así hoy se felicitan porque disponemos de seiscientos rastreadores en euskadi hoy que el rastreo de casos es casi imposible porque la transmisión del virus es comunitaria qué habría sido de esa incidencia de casos en euskadi de haber contado con esos seiscientos rastreadores en julio

reconoce que el rastreo de positivos y contactos como una de las herramientas más eficaces para frenar una cadena de contagios que hoy pretenden detener limitando nuestras libertades y arruinando nuestra hotelería y los servicios que de ellas dependen

le agradezco su disposición siempre a informar en comisión

atendiendo a esta interpelación sin duda una magnífica oportunidad para que en esta cámara nos explique los porqués y los paraqués sí también para qué

pero con algo más de detalle con algo más que un genérico doblegar la curva o controlar la pandemia eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea

legebiltzarkideok egun on cuáles son los criterios científicos

de su gobierno para frenar los contagios por covid diecinueve en el país vasco

sumando a la actual crisis sanitaria una profunda crisis económica

es la literalidad de la pregunta formulada sorprende

nos pregunte sobre qué criterios científicos sostienen que se tomen medidas para frenar

sobre la existencia de consejos de expertos o sobre la propia existencia de esos expertos y expertas en su propia intervención

a los miles y miles de pacientes que han acudido a nuestros ambulatorios consultorios urgencias hospitales o uci aquejados por la pandemia entiendo que se refiere a las medidas para contener la expansión del virus

laboral educativo social o de ocio la respuesta a la pregunta tiene enfoques diferentes

la experiencia humana científica y estadística de que miles de personas se están muriendo en el mundo afectadas por un coronavirus de nombre sars cov dos

la experiencia de miles de personas que han pasado por la enfermedad y cuenta con el sufrimiento vivido

de diez millónes de personas afectadas en todo el mundo hay ya una infinidad de laboratorios en todo el mundo luchando a contrarreloj para elaborar una vacuna

toda la investigación y literatura científica generada en el mundo durante todo un año sobre la naturaleza del virus sobre los diferentes efectos que tiene sobre la salud humana y sobre las formas en las que se propaga no hay más que acercarse a cualquier informe de la organización mundial de la salud la oms

en euskadi para hallar evidencias científicas de lo que está ocurriendo

gotas de gran tamaño que se emiten al hablar cantar toser

y que pueden impactar en los ojos fosas nasales o boca de otra persona a menos de un metro

pueden permanecer en suspensión en el aire pueden infectar

pueden ser respiradas en proximidad cercana o compartiendo el aire en espacios cerrados contacto directo o primario

generalmente un objeto o superficie que ha sido tocado por una persona infectada

generadas por una persona infectada y que luego toca a otra persona es obvio en qué entornos sociales se producen con más frecuencia situaciones que favorecen esas vías de transmisión

si no se respetan distancias medidas de protección y no se mantienen círculos pequeños y cerrados de relación hay otras vías de contagio

tenemos además la experiencia directa de los y las profesionales de la sanidad pública vasca la de esas personas que llevan un año luchando contra la pandemia

vacunando contra la gripe para evitar la concurrencia de ambas enfermedades pregúnteles si hay evidencias científicas que justifiquen las medidas de protección individual

pocas veces se habrá conseguido en este mundo globalizado

y social como sobre la necesidad de luchar contra la pandemia usando todos los instrumentos que están a nuestro alcance inversión en atención inversión en prevención asumiendo las consecuencias que ello tiene en nuestros modelos de vida

y en la marcha de la economía solo algunos imprudentes en el mundo han antepuesto la economía a la vida de sus ciudadanos y ciudadanas algunos de ellos lo han sufrido en sus carnes y han rectificado otros países

confinados en la responsabilidad social colectiva de su ciudadanía pero también les ha llegado la pandemia y también aplican medidas similares a las nuestras

no conozco experiencia en el mundo que haya resultado efectiva en la lucha contra el virus que no esté afectando gravemente

claro que hay miles de informes claro que hay miles de informes también de la oms

señora sagardui hoy es noticia el hospital de basurto y donosti seguimos aumentando los focos de contagio incluso en las zonas sabe usted que ha salido en el correo lo que yo y miles de vascos y españoles queremos saber y estamos ansiosos por saber cuál es el plan de euskadi el bueno el de verdad el que nos va a sacar de este atolladero o por lo menos nos va a ofrecer alguna volverán a abrir los bares volveremos a cruzar límites municipales

volveremos a las andadas el virus volverá a viajar con nosotros y ustedes volverán a limitar nuestros movimientos y nuestros derechos porque hasta ahora ese ha sido su único plan

lavándose las manos ahora que la gestión se complica y dejando la solución del problema en manos de presidentes autonómicos ansiosos de mandar en su territorio

ese que a principios de octubre decía que nuestra situación era moderadamente buena pero que no había que relajarse entonces en euskadi los rastreadores rondaban los trescientos pero podían haber sido muchos más de habérselo propuesto y de haber recurrido a los servicios expertos que el ejército puso a su disposición pues bien el plan bizi berri segundo planeaba la necesidad de incrementar la realización y así se ha hecho aprobado planteaba la conveniencia de reforzar el rastreo de casos y contactos

cuando el número de casos era rastreable y les pilló el toro a ustedes y por extensión a todos nosotros así que el suspenso en esta materia es innegociable y planteaban leo textualmente modular e implementar todas las medidas de respuesta comunitaria de regulación de actividades

del contagio o a combatir las actitudes y actividades que propician su propagación y aquí la verdad que no sé cómo puntuar porque la inconcreción del texto les deja bastante margen de maniobra así que lo vamos a dejar en manos de la ciudadanía

le suspenden sin paliativos además aunque es verdad que su televisión

solo salgan quienes alaban su gestión o piden medidas aún más duras y restrictivas

pero seguro que sería tan ineficaz como sus predecesores porque lo que necesita españa es un plan nacional una estrategia global para acabar con la proliferación de mini planes y nanoplanes hasta el punto de que galicia

cuando ya era imposible que los gallegos entraran en asturias o castilla y león

necesitamos una estrategia de país y no más autogobierno yo sé que no sería rentable para los intereses del pnv y de su socio de gobierno

para quienes vivimos en la más absoluta incertidumbre y aquí no cabe otro responsable que quien toma las decisiones en este caso el labi

decía que la ciudadanía necesita un plan y una estrategia nacionales y necesita también certidumbres certezas necesita

eficaz que cerrar bares y restaurantes es la mejor de las opciones posibles que nuestros hijos e hijas están seguros en el colegio y que no dejarles practicar deporte

que los guantes de plástico de nada sirven y que para estar seguros hay que pasear por el monte con mascarilla pero la realidad es que nadie sabe

tal vez de ahí venga la opacidad con la que están gestionando la toma de decisiones más que una necesidad de la ciudadanía deberían considerar una obligación la transparencia

algo tiene que ocultar en resumen necesitamos transparencia certezas y un plan nacional un plan en españa no uno en el país vasco y otros dieciséis más permítame una última referencia a su fallido plan dice textualmente la divulgación social del plan bizi berri es una de las medidas que cabe considerar relevantes porque la pedagogía social de rigor y corresponsabilidad tienen un carácter estratégico

de debates y de las motivaciones de decisiones que arruinan a miles y miles de personas eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea sagardui andrea zurea da hitza

presidenta andrea le recomiendo

en esta misma sala recordamos cuál era la valoración que hacía la ciudadanía de euskadi tanto de la gestión de la pandemia por parte del gobierno vasco

muy alta muy alta o usted se queda en ese tanto por ciento mínimo que decía que no es así pero le recomiendo que se lo vuelva a leer es más si no recuerdo mal yo creo que su

desde entonces hasta hoy han pasado muchas cosas se han tomado muchas medidas en todas las comunidades autónomas con el objetivo de reducir la propagación del virus andalucía murcia madrid

le suenan no voy a entrar en el debate ideológico que usted sí quiere abrir

pero sí hay algo que todos y todas tenemos claro y eso es cuál es la visión que el partido de la representante del grupo mixto tiene sobre la vertebración territorial del estado y sobre la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en este caso en materia de salud

siempre la cuestión es muy sencilla desde su óptica centralista y uniformadora cree que hay evidencias científicas que justifiquen las medidas de limitación de la actividad para frenar la propagación del virus en andalucía

gobiernos que ustedes apoyan cree que esas evidencias sirven igual para justificar las medidas que tomamos en euskadi

eskerrik asko presidente andrea sailburuak bueno a nivel de la comunidad

ha adoptado una serie de medidas restrictivas algunas de ellas de carácter muy restrictivas para contener la expansión

el veintiséis de octubre y como todos sabemos limitaron las reuniones a seis personas el toque de queda se quedó a las once de la noche había un margen para adelantar o atrasar

de euskadi no solo de euskadi sino también la imposibilidad de movernos entre las provincias y por lo tanto cada ciudadano no salir de su municipio salvo algunas excepciones sí que nosotros en su momento y lo he dicho aquí en esta tribuna en varias ocasiones

se nos había dicho que los límites y las limitaciones perimetrales no tenían sentido y este critero se varió en una semana pero también hemos estado acostumbrados a lo largo de todos estos meses a que se varíen criterios y la anterior

pero lo quiero poner de manifiesto también para que se vean los propios cambios de criterio

en la propia ciudadanía sobre cuestiones muy básicas como puede ser también el uso de las propias mascarillas no eran

son tan obligatorios que hasta para intervenir cosa que obviamente no voy a cuestionar ni mucho menos

los cambios de criterio que hasta para intervenir en esta tribuna también hace

y ahora la tenemos que hacer con mascarillas el segundo paquete de medidas estas no las anunció usted las anunció el lehendakari ya nosotros dijimos que

el propio lehendakari parece ser que así lo consideró

esta segunda vez y el seis de noviembre la pasada semana el jueves se anuncia la medida más restrictiva de todas que es el cierre de la hostelería con un gran impacto y además

con vamos con todo respeto señora consejera de forma adecuada se hizo un jueves cuando obviamente no se dio capacidad de reacción

a repartir y cuando también los propios el sector de la hostelería ya tenía comprado

servicio a las cuestiones que tenían contratadas para ese fin de semana sin duda esta medida

de la hostelería uno de los directamente castigados por esta medida con el impacto que eso acarrea a su propia economía y a la propia dinamización

ciudades y al sector económico también de todo euskadi la estrategia del departamento de salud hasta la fecha ha sido

llegando incluso a hacerse cribados masivos como todos conocemos poblacionales generalizados en municipios enteros o en algún barrio concreto como sucedió también en vitoria

parte de esta estrategia se basaba en el estudio de contactos o se basa en el estudio de contactos rastreo a partir de los positivos que hayan podido ser identificados con el fin de interrumpir la cadena de transmisión este rastro hay que decir que no es fácil porque supone un gran esfuerzo a los profesionales que lo realizan y no es fácil llegar a toda

que requiere un seguimiento de estas características y a la vez también bueno pues ha puesto sobre la mesa que se están retrayendo también

asistenciales en ámbitos que podrían ser necesarios lo que nosotros queremos

esta estrategia la estrategia puesta en marcha por el departamento de salud que usted

en marcha desde hace meses con las variaciones también por todos conocidas se ha basado

bueno en los últimos meses o específicamente en la gestión de la segunda ola de la pandemia como decía

de pruebas masivas especialmente pcr para detener

y luego el propio rastreo para poder detener la cadena de transmisión del virus una vez que se ha detectado un contagio pero tenemos que decirle que los datos que hemos analizado y que están encima de la mesa proporcionados por su

a partir del día cuatro de noviembre el número de contactos se ha ido incrementando llegando al día seis

tras un descenso los días ocho nueve y diez de noviembre por debajo de los mil cuatrocientos los últimos días el once y el doce de noviembre es decir ayer y antes de ayer

a este hecho o a estos datos mejor dicho se suma el hecho preocupante

hospitales el virus hay que decir claramente que se ha vuelto a colar en los hospitales vascos con consecuencias muy muy perjudiciales y consecuencias como decía que nos preocupan porque además esos focos parece ser controlados porque el número de contagios tanto en los profesionales de estos centros sanitarios como en los pacientes

así tenemos brotes en hospitales concretos en el de gorliz

hemos conocido la noticia de un fallecimiento de un paciente treinta pacientes contagiados en donostia hablamos de ciento treinta y cinco sanitarios infectados que además brotes se han detectado en unidades que requieren una atención especial a los enfermos

y en hematología las cifras en este hospital van aumentando porque parece ser que el brote el foco no está controlado y en basurto también un brote en la unidad de hemodiálisis

más dos pacientes afectados este brote este foco fue detectado ayer y también parece ser que el número de infectados tanto en sanitarios como en pacientes puede verse incremento parece ser que estos brotes

hospitales lo cual suscita obviamente unas preguntas obvias es el control de acceso a los hospitales de las personas que van de fuera señora consejera eso es una pregunta que está ahí y obviamente el control de las visitas a los hospitales no se está haciendo de forma

por otra parte también se pone de manifiesto con estos contagios y con estos nuevos focos en los hospitales la adecuación de los equipos de protección a nuestros profesionales están siendo bien protegidos los

parece ser que no el otro día y uno de los colectivos más afectados

por estos contagios es el colectivo de enfermería y las auxiliares de enfermería

propio sindicato de enfermería satse nos decía que ellos están reclamando sistemáticamente

proporcionando y en ese sentido que la protección no era la adecuada y total a este personal por lo tanto vemos que la historia de contagios en los hospitales se repite

más cansados más agotados y obviamente con unas consecuencias también

en la atención que se pueda dar a los pacientes puesto que afecta a los profesionales sanitarios también nos preocupa la situación de los hospitales

de ingresos en uci que van aumentando de la semana pasada a esta concretamente se pasó de un treinta y ocho por ciento del total de camas de uci ocupadas a un cincuenta por ciento y por lo tanto señora consejera a la que unimos también los contagios en residencias que van aumentando que esos focos

más la realización de pruebas diagnósticas más un estudio de contactos rastreo medidas decaladas impulsadas por su departamento que parece que no están dando los resultados esperados si ustedes se plantean hacer cambios en la estrategia diseñada y que está aplicando el gobierno vasco

en la comunidad autónoma del país vasco para el control de la pandemia no ha producido los resultados esperados dice usted señora garrido pues yo entiendo que sí que ha producido resultados

hay algo que no podemos saber pero podemos suponer y es

solo tenemos que recordar qué ocurrió durante los meses de febrero y marzo

medios materiales ni los instrumentos legales para contener la movilidad y la actividad que facilitan el contagio estamos acostumbrados

en la que si no se hace mal si se hace tarde o sin planificación si se hace a tiempo excesivo

de la pandemia y el proceso de desescalada nos han enseñado a todas las comunidades autónomas y países de nuestro entorno unas cuantas cosas

la efectividad de algunas de las medidas adoptadas y la necesidad de conjugar la aplicación de las medidas de control de la propagación

cultural laboral docente económica con la vida normalizada de las personas en definitiva de ahí esa experiencia

y en el conjunto del gobierno vasco para diseñar el documento bizi berri

ya hemos explicado aquí reiteradamente el esfuerzo que se ha hecho para dotarnos de más personal sanitario para realizar miles y miles de pruebas diagnósticas cada día para crear

protocolos que permiten ir disponiendo de más camas hospitalarias y camas uci a medida que aumenta la atención en la red de nuestro sistema de salud

planificación protocolo y disposición de recursos

conocen el plan bizi berri el plan se centra en ordenar la respuesta comunitaria

con este virus hasta que se resuelva la pandemia y con otros virus o agentes patógenos en el futuro si se diera el caso está alineado con las mejores prácticas internacionales en el marco europeo de actuación y se actualizará

está centrado en articular la necesaria adaptación de las actividades sociales la respuesta comunitaria los compromisos y la corresponsabilidad que de hábitos y comportamientos sociales requiere la covid diecinueve por parte del conjunto de la ciudadanía es un documento vivo que en cada momento ha de ir modulándose para adecuarse a la realidad una realidad cambiante como el propio comportamiento del virus

la estrategia diseñada desde bizi berri para hacer frente a la propagación de la covid diecinueve

pero hay que dar tiempo para que las medidas tengan su efecto la valoración que hacíamos hace una semana para la reunión del labi del cinco de noviembre

se apreciaba una disminución progresiva de la incidencia lo que se interpretó

que era rápidamente ascendente en fechas anteriores no vale dar solamente el número de positivos hablemos también

la tasa de incidencia acumulada razón de tasas irt apuntaban en una misma dirección las medidas adoptadas sumadas al mantenimiento del rastreo habían conseguido modificar

pero sin conseguir un efecto suficientemente intenso y desde luego sin percibirse que nos estuviéramos acercando a la cúspide de esta segunda ola

por lo que se refiere al impacto en el ámbito asistencial el número de ingresos estaba muy lejos del observado en la primera ola pero estaba ocasionando una creciente presión asistencial de hecho estábamos en el escenario dos de los cinco posibles

pero se estaba lejos de alcanzar la cumbre de esta segunda ola ascendente y menos aún del inicio de un descenso de las tasas de incidencia acumulada en catorce días le agradeceré que no hable en general de brotes en nuestros hospitales

de casos positivos y la aparición de brotes

nuestros hospitales cuentan con las medidas necesarias para la prevención de la propagación del virus pero se producen contagios como en otros ámbitos por supuesto

que requieren conforme a la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo

equipos de protección individual no están establecidos por esta consejera sino que esos equipos de protección individual están establecidos por los servicios de salud laboral y prevención de riesgos laborales

cuáles tienen que ser esos equipos y lo que sí le puedo garantizar es que esos equipos se facilitan a todo el conjunto de los y las profesionales

que era importante no demorarse no esperar acontecimientos y que eran aconsejables medidas adicionales

para aumentar el distanciamiento social disminuir la movilidad y las agrupaciones de personas y seguir identificando y aislando a las personas infectadas y a sus contactos la deliberación del labi como siempre intentó contemplar todos los puntos de vista y en el centro de debate la medida que mayor efecto económico y sobre el empleo podía tener el cierre de la actividad hostelera en la balanza

la necesidad de preservar la salud de las personas había que evitar la actividad en aquellos entornos no esenciales en los que la interrelación social informal y por tanto el riesgo de contacto y contagio es mayor en la comparecencia

ya les expliqué que esa visión relativa a la aplicación de restricciones está siendo compartida en el consejo interterritorial de sanidad cada comunidad

además euskadi no es la única comunidad que plantea más instrumentos legales por si fuera necesario tomar medidas más restrictivas

como también les informe anteayer en general la población está cumpliendo

sí parece que nos acercamos o bien a la cima de la progresión de incidencia o al inicio de la meseta previa al descenso que todos y todas esperamos como resultado de las medidas tenemos una estrategia

y también los países de nuestro entorno y todos ellos la van aplicando según evolucionan las circunstancias como nosotros hacemos en euskadi

explicaciones y su respuesta a esta interpelación que consideramos oportuna por una parte en relación a los

no sé si son los resultados esperados hablar de

del número de enfermos en planta cuatrocientos noventa y seis ciento treinta y dos personas en uci un cincuenta por ciento del total

era un treinta y ocho por ciento yo creo que esos datos no sé si son los esperados para la señora consejera o son resultados que puedan ser positivos desde luego nosotros sí que los vemos con precaución con cautela con precaución porque obviamente habrá que ver la evolución de los próximos

días nosotros no le hemos dicho que no tengan que adoptarse medidas pero es obvio aquí que podría plantearse un debate sobre las medidas

la sacralizada comunidad de madrid hace un mes en estos momentos se ha revertido claramente la tasa de contagios

y de mantener contacto en estos ámbitos pero lo que está claro es que con la hostelería abierta hasta las doce de la noche las cifras se han revertido hace mucho tiempo

medidas ahora como se han tenido que tomar en la comunidad autónoma del país vasco y que más allá de la discusión de la oportunidad de las medidas nosotros lo que hemos denunciado es que esas medidas no hayan ido acompañadas de la información suficiente de la previsión suficiente y de las ayudas correspondientes sobre todo cuando se ha perjudicado a un sector de forma

y ya me estoy refiriendo a dos medidas en el ámbito sanitario que es la realización de pruebas diagnósticas

de rastreadores capítulo aparte vale hablemos de focos si quiere usted no hablemos de brotes pero está claro que en los hospitales en estos momentos tenemos un problema

sanitarios contagiados es un problema o no es la cifra que se está dando y que se está dando hoy en los medios de comunicación y por lo que yo sepa el departamento de salud no lo ha desmentido ayer

a la mediodía y a la tarde y ocupó un lugar muy destacado en el teleberri

a la oposición en este caso cómo se detuvo en los focos de estos hospitales y hablaba claramente de focos del foco de górliz de basurto y del hospital donostia y centró mucho tiempo

del teleberri por lo tanto no creo que sea señora consejera

le prestó bastante atención por lo tanto yo creo que también

correspondiente de qué está pasando en nuestros hospitales porque la historia de nuestros hospitales se está repitiendo y usted no estaba en ese momento

por donde se empezaron a producir los contagios y en concreto en vitoria fue el foco del hospital de txagorritxu y luego aparecieron otros focos también en otros hospitales por no decirle la situación tan dramática

en nuestras residencias por lo tanto cuando me dice que hemos aprendido pues yo no sé si hemos aprendido mucho pero no sé si hemos puesto en práctica todas las medidas necesarias para paliar

y muchos de los problemas que se detectaron y que se estaban produciendo en esos momentos y que ahora siguen siendo problemas

de los profesionales que nos dicen que no se están dando las mascarillas adecuadas las efe pe dos y por qué entonces los profesionales se contagian en nuestros hospitales si la protección es la adecuada no tendría que haber contagios en los hospitales

claridad liderazgo criterios claros y previsión

recordarán que aquí fuimos los primeros en cerrar los colegios y se adoptó esa medida en primer lugar en vitoria y en álava con varios colegios y luego se extendía a toda euskadi y ahora en un escenario en el que había que tomar medidas muy drásticas no se ha optado por cerrar los colegios

y que se están haciendo de forma ordenada simplemente se lo pongo de ejemplo

que ha habido falta de previsión y que ha habido falta de criterios claros a la hora de abordar esta
crisis de la pandemia por parte del departamento de salud eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

si no se hace malo si se hace tarde y sin planificación y si se hace a tiempo

mire señora garrido creo que hemos aprendido y usted también ha aprendido y ha aprendido a leer los datos como hemos hecho el resto de la ciudadanía también y como hemos hecho nosotros luego

una incertidumbre allí donde no la hay cuando habla del número de positivos contextualícelo y cuando habla de que décimos que han tenido efecto

hospitales hay infectados profesionales

no lance el titular que es lo que gusta el titular aquí lo más difícil lo más importante en estos momentos es conciliar la necesaria activación

cultural laboral y económica con las medidas de contención que estamos implantando en toda europa con intensidad en toda europa con intensidad

pero esta segunda ola ha alcanzado ya a casi todo el mundo conocíamos y conocemos las medidas para frenar el virus sabemos que son eficaces

es ir adecuando la intensidad de esas medidas a los niveles de contagio que registramos cada día y que nos dan la medida de la evolución de la enfermedad y de la tensión que sufriremos pasados unos días en nuestros servicios sanitarios y eso también sabe usted interpretarlo

no las contemplamos pero como usted conoce se puede aumentar más la intensidad de las medidas de restricción de la movilidad y la actividad esperemos

y las plantea en el estado español queremos no llegar a ello lo que no nos quita

solicitáramos que se habiliten los instrumentos legales necesarios para decretar niveles superiores de confinamiento ni lo deseamos

nos gustaría tener el instrumento para actuar con celeridad y no solo a esta comunidad autónoma por último contemplamos cómo se está generando una importante expectativa en la sociedad vinculada a las informaciones sobre la cercanía

hay varias vacunas en un proceso de estudio clínico muy avanzado sí es de una previsión incluso que apunta al mes de enero como mes de la llegada de las primeras

parece que está a la vuelta de la esquina pero hará falta bastante más tiempo para que se generalice al conjunto de la población

un fracaso colectivo sí que es necesario seguir insistiendo en mantener las medidas de prevención en evitar la relajación
y en cumplirlas la estrategia es una y está dando sus frutos eskerrik asko eskerrik asko

quédate en casa restricción de la movilidad a las diez se recomienda no quedar con personas con las que no convivas todo muy bien pero si no te puedes quedar en casa qué pasa si tu casa no es segura qué pasa si convives con tu agresor qué pasa

dakigula la cosa se complica cuando no pueden pedir ayuda ni por teléfono cuando no pueden acceder personalmente a los servicios sociales de base y

pues que sigue aumentando el riesgo el control y la impunidad cuando están diseñando medidas que no tienen en mente a una parte importante de la población bueno supongo que será porque igual en sus comités de expertos como el labi hay poca perspectiva feminista

si décimos quédense en casa acompañémoslo de quédense en casa seguras aprendan de las campañas de otros países

para las mujeres que viven situaciones de violencia hagan sobre todo medidas si los datos indican que durante los tres meses del confinamiento las denuncias de violencia contra las mujeres descendieron no fue porque las agresiones descendiesen sino porque las mujeres no tenían

de denunciar por las vías establecidas eso y que muchas veces las mujeres no se sienten seguras denunciando agian erantzukizun pixka bat dugu

pero la coyuntura ha cambiado estamos en una pandemia necesitamos medidas eficaces para detectarla y los canales y las formas en que nos llegue la violencia se hace más invisible nos lo han dicho las trabajadoras sociales las psicólogas

son las propias mujeres al no ver claro ni dónde ni cómo ni cuándo ni cómo salir de su situación las que generan sus propias estrategias de contención

se convierten en horas de supervivencia y autoprotección eta horrek administrazio gisa gobernu gisa justizia berdintasun eta gizarte

egiten duguna erregulatzen ari garen ala ez del confinamiento de marzo mayo hay varios informes oficiales de emakunde o de la diputación de gipuzkoa que aportan datos

lo detectado y también lanzan hipótesis coherentes sobre este tema estos informes destacan pero sobre todo las profesionales de este sector que hubo grandes fallos que hay que atajar la formación del personal

los itinerarios para la denuncia la propia oferta habitacional

la desigualdad de territorios o municipios a la hora de implementar recursos

y no tenemos medidas y esto es una negligencia eso o que les importa poco la violencia machista pero qué está pasando cómo es que el gobierno no ha sido capaz implementar algo tan sencillo con un canal de whatsapp y qué ha pasado con las quince medidas a las que llegamos a un acuerdo

todas ellas encaminadas a prevenir y detectar la violencia machista por qué no se contemplan las recomendaciones que desde sus propios organismos han hecho porque lo que estamos viendo agravado no es nuevo porque las mujeres

nos vemos confinadas tele trabajando y además asumiendo la responsabilidad de cuidados podríamos identificar como ya lo hace emakunde incluso prevenir

para grupos de mujeres que sabemos tienen un alto riesgo de sufrir algún tipo de violencia por ejemplo las mujeres con discapacidad o las mujeres que sufren enfermedad mental o las que son objeto de la campaña de emakunde de este año para el veinticinco de noviembre las mujeres de edad avanzada así mismo las mujeres migrantes las refugiadas las solicitantes de asilo y retornadas las víctimas de trata y de explotación sexual otra violencia que se ha disparado es la violencia

todas hemos sido conscientes de que cuando se ha querido se ha podido y hay algunos ejemplos positivos de coordinación interdepartamental durante el confinamiento pasado

y la prevención de violencias machistas no se vieron reforzadas como deberían y eso es a lo que les interpelamos desde mi grupo parlamentario ahora no deberíamos de estar usando recetas que vimos que no eran

de las mismas tenemos experiencia e informes que avalan que hay que analizar las conductas de violencia machista producidas en un contexto novedoso y que los servicios de atención a las víctimas de violencia no están adaptados

y sobre todo de la formación de las personas que trabajan en este ámbito eta indarkeria matxistari aurre egiteko aurrekontua indartzea lehen ere garrantzitsua bazen

ikusteko zain gaude y es que a la hora de dar una respuesta a las situaciones de violencia

y creo que en su departamento son conscientes de las dificultades que está teniendo el personal profesional de las diferentes instituciones para detectar las situaciones de violencia la demanda de formación

de recursos de los municipios más pequeños o que el automatismo de la denuncia y las complicaciones

perjudiciales para las mujeres o incluso que la coordinación interinstitucional no siempre es ágil y las puertas de accesos son limitadas así que

para que todas estas situaciones de violencia invisibilizadas y todas las carencias que han detectado las personas que trabajan en el ámbito de la prevención se vean paliadas con esta nueva

señora artolazabal cuéntenos cómo están ayudando o sosteniendo a esas mujeres que soportan la violencia machista en el contexto que vivimos eskerrik asko

cuáles son las medidas que desde el gobierno vasco en colaboración con las diferentes instituciones y asociaciones hemos ido poniendo en marcha ante esta situación tan complicada que han tenido que vivir y soportar las mujeres víctimas de violencia de género lo que sí quisiera iniciar mi intervención es diciendo que el sistema vasco de atención a las víctimas de violencia machistas respondió de forma adecuada

y esto además lo hicimos en colaboración y con el asesoramiento de emakunde porque emakunde le quiero recordar que es parte del gobierno vasco

de aquella situación nunca antes vivida en euskadi y en el resto del mundo confirmamos la importancia de tener esas estructuras y servicios consolidados y no hacemos mensajes señora gonzález sino que hemos puesto medidas y medidas concretas para atender estas realidades con presupuestos concretos

o interinstitucional permitió mantener abiertos todos los servicios intensificando un trabajo de coordinación asentado en el país vasco desde hace ya más de veinte años un acuerdo interinstitucional de coordinación que ha sido clave en la respuesta y que unido a una estructura asentada y fuerte nos ha permitido responder ante esta situación desconocida

y este hábito de trabajo interinstitucional y multinivel ha sido clave en la respuesta en este contexto inédito con esta

pandemia en la primera ola vamos a seguir trabajando

contacto con las instituciones que dan respuesta a la violencia contra las mujeres presentes en la comisión de seguimiento del segundo acuerdo interinstitucional también desde el departamento de igualdad y emakunde continuamos liderando la comisión de seguimiento y se continúa trabajando coordinadamente hemos reforzado la difusión de satevi nuestro servicio especializado de información y atención veinticuatro horas a mujeres víctimas de violencia que como sabe

telefónica atendido por profesionales especializadas

y a personas también con discapacidad auditiva o del habla mediante un canal específico que está a punto de implementar una importante mejora

satevi ya atendía no solo casos de mujeres víctimas de violencia de género ejercida por pareja o expareja sino también que atiende a situaciones de violencia física

sexual o por omisión de cuidados por parte de algún hombre de la familia

la prostitución forzada trata de mujeres y niñas mutilación genital femenina matrimonios forzados etc como ven satevi se ajusta al convenio de estambul

atiende a todas las mujeres víctimas y también a sus familiares o personas allegadas a estas y a profesionales que demandan la información de asesoramiento y durante la primera hora de la pandemia

recordarle que hasta el pasado mes de octubre el dieciséis era un servicio que solo era para violencia de género

y según fuentes del ministerio de igualdad a partir del pasado mes de octubre el dieciséis pasaría a ser un servicio de atención psicológica y acompañamiento emocional

ese camino lo teníamos recorrido hace ya muchos años a nivel estatal durante el confinamiento

y esto quiero decirle que no sé si le parecerá que es la mejor

poniendo en marcha muchas otras herramientas para atender a estas mujeres

a través del equipo multidisciplinar que atiende este teléfono que está formado por psicólogas educadoras y trabajadoras sociales y quisiera aprovechar esta tribuna para agradecerles su trabajo y profesionalidad

el servicio complementario de atención psicológica de las instituciones forales que realizaron una encomiable labor con miles de intervenciones de apoyo durante la primera ola de la pandemia los servicios forales siguieron atendiendo a todos los casos activos e iniciaron

en esta segunda ola se ha vuelto a realizar una difusión masiva de la información de los teléfonos novecientos ochocientos cuarenta ciento once y el teléfono de emergencias

hemos publicado también material en distintas lenguas y a través de nuestra colaboración con la coordinadora edeka se han adaptado los materiales para poder llegar de manera eficaz y efectiva

hemos puesto en marcha una campaña contra la violencia más oculta y dirigida específicamente a mujeres de mayor edad

creemos que esta campaña va a suponer un avance en la detección de casos y va a ayudar a acercar a las mujeres mayores a los recursos ya existentes

de una vez descargada dar cuenta de la emergencia sin llamada telefónica apretando un botón que permite la geolocalización

están identificados los casos de riesgo y se han intensificado las contravigilancias

las coordinadoras de caso han contactado después con ellas para valorar cada situación en este complejo contexto

la tramitación de estas ayudas de estas solicitudes se simplificó habilitando de manera telemática a través de un correo electrónico específico la posibilidad de hacerlo más rápidamente

presupuestaria ampliada en estos presupuestos del año dos mil veinte

más del ochenta por ciento hemos reforzado también la difusión del teléfono zeuk esan el ciento dieciséis ciento once que es el servicio de atención

contra las niñas y mantenemos también contactos con asociaciones de mujeres víctimas y supervivientes de la violencia para conocer sus necesidades específicas

y se han incluido aspectos relacionados con la pandemia en la formación online para profesionales que intervienen en casos de violencia contra las mujeres así señora gonzález verá que el sistema está respondiendo ante una situación inédita nunca antes vivida

no obstante en nuestro afán de mejora continua seguimos trabajando para preservarlo y reforzarlo de cara a dar respuesta a los desafíos que van surgiendo

como le decía en esta situación difícil hemos confirmado la importancia de tener estructuras consolidadas

fuertes para atender a las mujeres víctimas de violencia hemos comprobado que contar con una fluida coordinación clave en tiempos de pandemia y para concluir esta intervención me atrevo a decir que hemos sido ejemplo en el estado español y es que compartirá conmigo señora gonzález que en el estado los recursos empleados para prevenir y atender la violencia machista son sensiblemente inferiores a los de euskadi en esta situación de pandemia mila esker

artolazabal sailburua hay una cuestión sobre la que queremos atraer su atención y que nos parece vital para consolidar la transversalización de la equidad de género en todas políticas que emanan del gobierno y de esta cámara

comunican y diseñan respuestas a esta pandemia ignorando que la violencia machista sigue igual de activa y que también se transforma cuando las dinámicas sociales cambian

obvian por ejemplo que la presión sobre cómo llegar a fin de mes la sobrecarga de los cuidados y el estrés emocional pues también impactan sobre las violencias machistas y que son factores que hace que esta aumente

tampoco vemos ningún mensaje claro de cara a la ciudadanía sobre el rol comunitario comunitario y preventivo en este sentido o sea de acompañamiento el que juegan las asociaciones

de las mujeres nuestras vecinas nuestras amigas las que pueden sostenernos

que tenga relaciones sociales estos días fuera del entorno convivencial que es una irresponsable y bueno aun entendiendo que son mensajes que son necesarios

las personas que sufren violencia machista y que oigan este discurso tampoco van a estar seguras van a sentirse incluso más inseguras porque no es tan importante quedarte en casa para no contagiarte del virus como quedarte en casa

porque la covid es igual de pandémica que la violencia machista

y que toda la sociedad y las mujeres sepan con seguridad a qué tienen derecho y con qué apoyos pueden contar es muy importante

pues lo que usted dice muchos canales muchos teléfonos muchas campañas realmente lo que dicen los informes del primer confinamiento es que a muchísimas mujeres eso no les llegó

además bueno creemos que es imprescindible trabajar sobre fallos estructurales no que nos mostró la primera ola por ejemplo

la falta de coordinación o las puertas de acceso

municipal los servicios sociales las organizaciones de mujeres del municipio

o por ejemplo señora artolazabal la estrategia de las personas sin hogar que fijaba una directriz sobre los recursos de acogida para mujeres sin hogar no mixtos porque en la calle hay mujeres que sufren muchísima violencia y hubo mujeres que se les derivó a espacios mixtos

del anterior confinamiento es el retraso que lanbide acumuló para atender citas previas y el ararteko

llamamiento sobre esto los servicios sociales de base desbordados

se aumenta la precariedad y los colectivos y perfiles que recurren a los servicios sociales los oídos de las personas que tienen a estas personas deben no estar sobrecargados ni saturados están demandando más formación en este sentido

yo creo que el ministerio fue el primero que impulsó a nivel institucional un servicio de whatsapp el whatsapp no es lo mismo estamos hablando de cualquier vía telemática

dé un punto de privacidad a la mujer que quiere decir que lo está pasando mal

y por último allí donde no vamos a llegar las administraciones

y estas asociaciones ahora mismo están viendo un acceso a fondos limitado

usted comentaba lo de en la comparecencia en la comisión de políticas sociales el aumento del treinta por ciento en políticas de igualdad y que treinta millónes se van a invertir en gasto para la erradicación de violencias machistas y hemos visto en juntas y en ayuntamientos cómo no se está

recuperen el peso que debieran de tener en la agenda política

señora gonzález el tiempo es escaso para poder debatir de esta cuestión que a todos y todas las que estamos en esta cámara nos preocupan y de verdad creo

en esta cuestión estamos todos de acuerdo lo que pasa que tenemos que ser bueno pues realistas a la hora de decir las cosas

en valor todo lo que se viene haciendo nunca han perdido las políticas de igualdad su protagonismo en este gobierno

además así lo han reconocido muchos agentes y no creo que es justo que digan que recuperemos lo que nunca jamás hemos perdido creo que

instituciones y también desde los diferentes departamentos que hemos ido poniendo

medidas concretas ayudas concretas no solo teléfonos han sido llamadas ha sido formación a los profesionales y todo esto lo hemos hecho de la mano de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión y con las mujeres que son víctimas de violencia de género señora

que sabe de esto y además es que nuestros propios técnicos también tienen el conocimiento y la formación para poder asesorarnos no vivimos en una burbuja no vivimos

lo hacemos además en colaboración y lo hacemos en coordinación con otras instituciones que están dando esta que están ofreciendo esta serie de servicios y le repito

que podemos hacer más seguro y para eso estamos trabajando tanto en la primera hora como en la segunda

y me gustaría parafrasear ahora la idea del fundador de amnistía internacional que él decía

que desapareciera su organización ya pero que todavía no estamos en esa situación

tenemos un problema complicado tenemos un problema que es

y que tiene que ser tengamos que atender cada vez mejor a estas mujeres que están sufriendo una situación muy complicada desde el punto de vista de la violencia de género que es una situación que desde luego no podemos permitir y la mayor desigualdad que existe en una sociedad

ese treinta por ciento y lo vamos a ver en los próximos presupuestos hoy mismo

y anunciaba la puesta en marcha de unos nuevos recursos para mujeres víctimas de violencia de género pues de eso se trata de seguir avanzando y de seguir subrayando

y mejorando las iniciativas que estamos poniendo en marcha

de acabar con esta situación de desigualdad que resulta contagiosa y además cuando hablaba

la estrategia de personas sin hogar no se habían tenido en cuenta la situación de estos colectivos eso no es cierto

puesto en marcha los diferentes recursos para confinar a las personas que se encontraban en calle tuvimos en cuenta también la situación de vulnerabilidad del colectivo de mujeres porque tienen una doble vulneración de su situación y eso lo hemos

esos recursos porque como además sabe no lo hicimos solo nosotros

en colaboración con las entidades del tercer sector que trabajaban en esta materia

que vamos a traer a esta cámara un proyecto de ley que va a prever el refuerzo de recursos económicos humanos y técnicos para desarrollar las políticas de igualdad que de forma complementaria vamos a trabajar en ese pacto social ciudadano contra la violencia y que confiamos que de forma inminente

para concluir yo sí que me gustaría decirle que como usted decía en su justificación de la interpelación en un contexto de crisis socioeconómica sanitaria

todas las medidas y programas reforzado los servicios y los recursos destinados a las mujeres víctimas de violencia que tenemos un sistema de protección que está demostrando ser eficaz que lo estamos haciendo en colaboración con asociaciones grupos políticos como el suyo que con sus enmiendas

iniciativas para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género mila esker eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hemezortzigarren

efectivamente como usted señala en la justificación señora kortajarena

para mejorar su situación cuya expresión fundamental la tenemos en la estrategia vasca de personas sin hogar

en esa evaluación de la estrategia que hemos realizado nos ha dejado una foto en la que se refleja que las medidas contempladas

yo ya le trasladé a la señora gonzález en el pasado pleno de control información en esta cuestión pero nos encontramos en una situación ciertamente transformada por la

ha tenido que ser actualizada en relación a lo que la pandemia nos ha tenido o hemos tenido que hacer

estamos trabajando de la mano con instituciones y entidades del tercer sector social hemos activado ya como usted sabe ya hicimos

trabajábamos con las agentes hemos activado ya esa comisión en esta nueva ola para

en estrecha colaboración con los distintos agentes para dar forma a las necesidades que derivan de la situación incierta sabemos de las realidades que se están produciendo en bilbao y en donosti y el objetivo común es identificar esas consecuencias para ver cómo somos capaces de adecuar tenemos el fondo

respuestas a esas necesidades en una situación extraordinaria como la actual eskerrik asko artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

usted debería saber seguramente ya lo sabe porque tiene las funciones de liderar la estrategia de personas sin hogar que la realidad es bastante más bruta

cómo encajan declaraciones como la del señor aburto o lo pasado en el infierno de donostia en plena pandemia que deja a sesenta personas en la calle

la relatora de naciones unidas comentaba hace bien poco en una visita realizada a nuestro país etxebizitza

para atender a las personas sin hogar bete zuen konpromisoak bete zuen

señora kortajarena nosotros cumplimos nuestros compromisos y como bien usted dice la vivienda es la primera medida

de la calle y por eso cuando la pandemia nos azotó tuvimos claro que teníamos que hacer algo en esta cuestión

ha servido para apoyar las iniciativas de entidades que junto con los ayuntamientos habilitaron refugios para las personas sin hogar durante el confinamiento domiciliario y lehen urratsa

que hemos diseñado con las instituciones para ofrecer alternativas de alojamiento con acompañamiento social a fin de reactivar o iniciar procesos de inserción a las personas que salieron de los refugios habilitados porque ya teníamos identificadas esas personas

para poder continuar en ese proceso de inserción en la sociedad estamos teniendo una oportunidad para profundizar en el conocimiento de cada persona estamos innovando en las respuestas estamos retomando poniendo en marcha itinerarios para sus procesos de inserción

y quiero subrayarle que hemos organizado dispositivos específicos para mujeres antes se lo decía también

gonzález porque tienen esa doble vulnerabilidad que usted bien sabe vamos a seguir colaborando con el resto de las instituciones vamos a trasladar la repercusión y las necesidades que se han detectado y que ya sabemos y gracias a toda esta labor de colaboración interinstitucional y con el tercer sector se han atendido a más de mil personas desde lehen urratsa nuestra intención

de este año y adecuarlas a la evolución de las necesidades siempre en diálogo con otras instituciones y con el tercer sector social

como sistema de responsabilidad pública y mixto con prevalencia de la gestión pública directa y a través de la iniciativa social en la evaluación de servicios sociales de las políticas de servicios sociales

de las inversiones o de los recursos están destinados al ámbito de la dependencia y por tanto es preciso tener en cuenta todas las realidades para poder hacer frente a todas las necesidades

es muy importante realizar ese análisis económico de sostenibilidad

iba a significar que debemos promover un equilibrio en el cuidado institucional y familiar en favor del primero del institucional

fue lo que literalmente les dije y buscamos asegurar que las personas que lo deseen puedan seguir residiendo en su domicilio esto es algo que también todos compartimos

insisto cuidados informales con apoyos de servicios formales y eso señora etxebarrieta no es apología de los cuidados en el núcleo familiar

en el itinerario vital de las personas mayores y esto exige reforzar los apoyos a las personas cuidadoras fortaleciendo el cuidado institucional y la implicación también de los hombres pero también hay que tener en cuenta la inversión económica que tenemos que afrontar

nuestro objetivo será poner por tanto los cuidados en el centro de las políticas para poder avanzar en una organización social cada vez más corresponsable y hacer efectiva esa transición

y económicamente en el que es preciso equilibrar los cuidados institucionales y los cuidados informales eskerrik asko artolazabal andrea

como dice amaia perez orozco es imprescindible denunciar que a los hogares se remite la tarea titánica la vida en un sistema que la ataca hay que hacer expresamente político todo lo que ya lo es pero que vivimos en gran medida como personal dejar de vernos

y de cobertura universal dirigido a toda la población responsabilidad pública y universal si garantizamos este derecho usted venía a entrever que a lo mejor nadie quería

pero no lo es necesariamente si pensamos este derecho como la garantía

a costa de su propia calidad de vida a hacerse cargo de un cuidado para el cual no existe responsabilidad social el derecho a no cuidar es la garantía de que nadie

y por lo tanto cuidadora innata o ser migrante y no tener otra opción laboral se le imponga la resolución individual de una realidad de interdependencia negándole su propia autonomía

esto lo vengo diciendo ya desde la legislatura pasada y este gobierno ya está impulsando numerosas medidas para poder avanzar estos cambios son largos y para ello necesitamos se vayan interiorizando por parte de la sociedad para poder hacerlo y para ello las instituciones tenemos que favorecer esos cambios y también tenemos que favorecer el desarrollo profesional y personal de las personas y que también sea compatible con ese cuidado en eso creo que coincidimos todos los que estamos aquí el cuidado

ese es el proyecto político que nosotros defendemos buscamos un nuevo equilibrio entre el

yo sí que creo que es fundamental y vamos a abordar los cuidados desde los principios de libertad justicia y solidaridad

y es un hecho cierto invierte en dependencia más del doble de la media estatal por habitante y año y creo que es preciso seguir realizando ese esfuerzo quiero trasladarles una visión positiva de los cuidados familiares y creo que

visto abocados a traer hoy aquí al pleno del parlamento esta interpelación dirigida a usted por ser consejero de comercio turismo y consumo

del cierre de todos los establecimientos de hostelería del país vasco como medida extrema adoptado por el gobierno al que usted pertenece y el señor lehendakari

sobre las posibles medidas para luchar contra la covid y en el último momento decide cerrar la hostelería generando un estigma sobre las medidas higiénico sanitarias de este sector ustedes

con la patronal de este sector por qué no se han estudiado otras medidas alternativas al cierre

por qué no han trabajado todos juntos con los hosteleros desde la empatía para buscar una solución que no fuera el cierre por ejemplo mesas de

cuatro personas el cierre a las seis de la tarde para incidir en los hábitos de la población

la hostelería ustedes no han querido trabajar de la mano

han dado sobradas muestras de sus ganas de innovar de sus ganas de reinventarse de dejarse la piel para poder levantar la persiana de sus negocios

y poder ganarse la vida los políticos debemos estar a la altura y no podemos fallar hace apenas unas semanas usted habló de una mesa

diputaciones el departamento de economía y trabajo el departamento de autogobierno los ayuntamientos de san sebastián vitoria bilbao

cinco mesas de trabajo en concreto pues mire

reunirse con los hosteleros para acordar el tipo de medidas evitando el cierre la misma semana que se constituye la mesa el gobierno

para coordinar un plan de rescate que acompañase la medida del cierre total de la hostelería pero no lo que han ido a sacar ha sido

treinta millónes para dar como máximo cuatro mil euros a cada hostelero

y le voy a poner un ejemplo de otra administración de otro gobierno el de francia y alemania y se ha repetido hoy varias veces

no esencial han articulado un rescate económico basado en la facturación del mismo periodo del ejercicio anterior es decir del año dos mil diecinueve

y quiero hacer mención a unas palabras que ha hecho el señor lehendakari extendiendo una ligera sombra sobre los hosteleros vascos me ha dado la sensación que quería decir

o que no facturaban todo o que no había que darles

alemania de facturación del año anterior no lo sé cualquiera de las dos soluciones me parece

un sector las decisiones políticas no pueden ser las responsables del hundimiento de un sector la hostelería y

a la pregunta de carlos iturgaiz pues me daba cierto o que ustedes quieren ser cicateros con el sector y tienen los medios pero no quieren

a la grave crisis que están fomentando con sus decisiones políticas

sean sinceros con nuestros ciudadanos que se lo merecen qué van a hacer en el caso de la necesidad del cierre del sector del comercio que supongo que en su escala de valores será el siguiente en la quema tampoco van a destinar ustedes al sector y diré que la estela de buena gestión se desvanece

tantas competencias y no son capaces de cuidar al pueblo que los sustenta y que pagan los impuestos con regularidad otras comunidades

por no hablar del paquete de medidas que han implantado algunas para acompañar las medidas restrictivas pues han demostrado una nefasta gestión en este momento no se merecen

no se merecen que unas decisiones políticas les arruinen y no me hablen de prestamos ico ni de nade de eso los hosteleros necesitan un respirador de urgencia

pues son el chocolate del oro ustedes se conforman con callar a la mitad del sector imagínese qué puede hacer un hostelero que paga veinte mil euros en seguros sociales

atajando el problema de raíz todo el problema simplemente unos cuantos además voy a decir

les han dejado las cuentas a cero porque han invertido para adecuar sus establecimientos y han pagado sus impuestos han rescatado a los trabajadores que han podido los erte porque la situación económica y la situación tensionada por las medidas acogidas por la covid no les han permitido rescatar a todos los trabajados de los erte vamos a ver estamos hablando sesenta y cinco mil familias sin ingresos es que ni la rgi va a ser capaz de darles

están trabajando con parches en estos momentos la hostelería necesita ser atendida en las uci repito y tanto su ruina como su reflote es que está en sus manos

de estas familias es que se dice rápido eh no han medido las consecuencias de sus decisiones pepito es el país vasco una comunidad solvente

de esta situación a las duras y a las maduras no sean cicateros con los hosteleros gracias eskerrik asko

el agravamiento de la pandemia en su segunda ola en el mundo en europa y en españa está obligando a tomar medidas que preserven la salud de las personas por tipo de expansión del covid diecinueve los expertos coinciden en que la mejor manera de frenar esa expansión es mediante limitaciones a la interacción social

que es firme desde el principio que la salud es lo primero en nuestro entorno se han tomado diferentes medidas si bien se está tardando de evitar confinamientos en domiciliarios como ocurrió en españa en marzo

comunidades limítrofes en otras comunidades y en la mayoría de los países europeos y aquí quiero dejar claro una cuestión el cierre de la hostelería en todos los lugares en los que se ha tomado esta medida

se toma en base a criterios sanitarios hemos esperado cuanto hemos podido manteniendo la hostelería abierta

porque somos conscientes de la importancia de este sector y tenemos que dejar claro autoridades sanitarias recurren al cierre de estos establecimientos es porque son lugares de socialización

nos relajemos y la prevención y el cumplimiento de medidas sanitarias no se cumplan de la forma más correcta

que está mostrando en todo momento una actitud colaborativa y responsable y aplicando siempre con rigor las medidas que le imponen las autoridades sanitarias

que evidentemente causa esta medida y tratar de paliar sus consecuencias tanto en materia económica como de empleo

caracterización precisa del sector la hostelería vasca es un sector de gran importancia en la economía del país

pero que tiene una situación singular que no se puede comparar con otras realidades nacionales o internacionales y que por lo tanto precisa de medidas específicas en euskadi el sector de la hostelería está compuesto por un noventa y nueve coma cinco por ciento de micro y pequeñas empresas y autónomos

y tres trabajadores tres mil doscientos veinticuatro una plantilla entre cuatro y diez personas y solamente seiscientos noventa y ocho que tienen más de diez personas empleadas

barajando diferentes escenarios según las posibles medidas que se adopten el pasado viernes seis de noviembre se publicaron las nuevas medidas acordadas por el labi que entraron en vigor el sábado

ya hemos presentado la orden del nuevo programa de ayuda a la hostelería vasca dotado con treinta millónes que se acumula a todas las medidas que ya están en marcha y lo hemos aprobado en el primer consejo de gobierno celebrado tras la publicación de las medidas adoptadas por el labi

las aprobamos ya en una orden con todas las garantías y garantías que se quedarán plasmadas con la publicación

del país vasco la semana que viene las nuevas ayudas a la hostelería vasca se unen a otras que se han puesto en marcha desde que se produjo la pandemia

los treinta millónes de euros de esta nueva convocatoria se suman a los veinticinco de ayudas extraordinarias a los ocho millónes de ayudas ordinarias y a los cinco coma siete millónes de bonos al consumo es decir setenta millónes de euros de los cuales cuarenta y cinco se dirigen específicamente al sector de la hotelería

que no hemos sacado ninguna medida sin antes hablar y tener una comunicación directa

tanto para los bonos como para la orden covid como para las ayudas en resumen las nuevas ayudas a la hostelería vasca cuentan con treinta millónes de euros nuevos y buscan apoyar al sector hostelero en un contexto de dificultad sobrevenido por la crisis del covid hemeretzi se dirigen a autónomos micro y pequeñas empresas

contribuyendo a paliar las pérdidas económicas y con ello el sostenimiento del empleo

firme de ahí que con el fin de garantizar ese empleo se solicite a los establecimientos receptores de las ayudas el mantenimiento de la actividad durante al menos cuatro meses

son ayudas directas a las empresas y compatibles con el resto de ayudas de otras administraciones y la aplicación de los erte los establecimientos que se acojan a ella recibirán tres mil euros si tienen

o menos personas trabajando tres mil quinientos euros lo que tengan entre cuatro y diez

soy plenamente consciente de que la eficacia de cualquier medida de este tipo radica en que llegue

y que el procedimiento de adjudicación y pago sea ágil y riguroso para ello

extra de veinte personas que se dedicarán exclusivamente a la gestión urgente de estas ayudas

este es uno de los programas de sostenimiento que desde mi departamento queremos dar al sector pero estamos coordinados por otro departamento del gobierno vasco con

solicitadas puedan ser gestionadas con la mayor celeridad a empresas y personas autónomas

esta micro y pequeñas empresas con unas condiciones muy favorables al cero por ciento de interés sin pagar nada el primer año

de que para superar la situación y que el sector de la hostelería vasca vuelva a tener la dinámica y la fortaleza que les caracteriza

entre todas las instituciones doy la bienvenida a las declaraciones de otros responsables institucionales forales o municipales a adoptar medidas de apoyo en el primer caso o la exoneración de ciertas tasas al sector

también es importante la ayuda que puede prestar el gobierno de españa con la prolongación de los erte

por nuestra parte además de adoptar medidas en función de las circunstancias cambiantes vamos a continuar con la línea de trabajo emprendida hace una semana en la mesa interdepartamental e interinstitucional abordando de manera extensa la problemática que suscitan todos los problemas del sector

adopción de medidas complementarias entre todas ellas evaluación de las adoptadas y revisión constante para mejorarlas

esa ha sido la tónica de trabajo que he establecido y con la que pienso continuar

desde el departamento vamos a seguir trabajando con la mano tendida al sector siendo su aliado también a otras instituciones coordinando nuevas medidas este programa de ayuda a la hostelería vasca es un nuevo paso que busca apoyar a más de doce mil empresas conformadas

por menos de tres trabajadores en su mayoría negocios familiares en muchos casos a quienes queremos llegar de forma directa y eficaz para ayudarles al mantenimiento de estos negocios y los empleos

mire señor consejero estamos a tiempo estamos poniendo todos por nuestros medios en este asunto

porque se le ve muy satisfecho con las medidas que se han tomado pero es que esta mañana estaban todos los hosteleros

protestando porque a ellos no les satisface porque esas medidas que ustedes han planteado

de que la situación es grave la situación económica a nivel mundial es grave sin embargo

con esos treinta millónes de ayudas que ustedes anunciaron el martes no vamos a conseguir que levanten la persiana porque

y además porque ya vienen de un profundo endeudamiento del confinamiento anterior que es un sector que ya venía con dificultades ahora

y mire nosotros lo que planteamos es un plan de rescate pero un plan de rescate en el que tienen que coordinarse con todas las instituciones y para eso está muy bien la mesa

ha hablado nosotros propondríamos en esa mesa un paquete de medidas y se las voy a detallar por si acaso le entran y además estas ayudas satisfarían

porque es parte de ellos de unos estudios que ustedes han hecho y que les vendría bien

por un importe de doscientos millónes de euros a cero ingresos cero impuestos es decir exenciones fiscales condonaciones de ibi tasas de aguas alcantarillado y todo esto se coordina con las

peticiones y mediaciones de acción ante el gobierno de la nación y ante las entidades bancarias para que o los propietarios de los locales para que

moratorias en las hipotecas quitas en los alquileres o simplemente medidas fiscales

no empeore la situación de quienes alquilan y no tienen otra fuente de ingresos y tienen

necesitamos transparencia claridad celeridad actuando todas las instituciones a una y no cada una por su cuenta es decir todos los hosteleros tienen que tener en el país vasco las mismas oportunidades y

moción hay demasiado en juego y ustedes no pueden permitirse

haciendo testimonialismo en vez de afrontar el problema de la hostelería en toda su dramática dimensión

y darse cuenta que con las medidas de apoyo que ustedes han propuesto

los hosteleros vascos necesitan que se apoye de verdad que se demuestre que se está apoyando al sector y que se demuestre que en un momento de crisis se les puede ayudar para que no se

es un plan de rescate bien argumentado que propone el sector de la patronal de los hosteleros y que lo necesitan como agua de mayo de verdad no les dejemos caer no necesitan más prestamos de elkargi para endeudarse más no la necesitan lo que necesitan es un apoyo real

vamos por partes yo creo que le he explicado de forma pormenorizada el trabajo que estamos haciendo y todas las ayudas que estamos poniendo sobre la mesa que se han puesto y que acabamos de traer el martes pasado

y es que no solo lo digo yo lo dice el propio sector si usted atiende a las comunicaciones que hacen

pero están diciendo el contacto es continuo y estamos hablando con ellos de manera permanente tanto yo como todo mi equipo con lo cual yo creo que tendrá que ceñirse a la verdad segunda respuesta rápida hombre

y nosotros se lo vuelvo a insistir el jueves se toma la decisión por la tarde

hace la restricción y el martes llevamos la orden hombre

de forma permanente y de forma coordinada dentro del gobierno y cuando se toma la decisión

por cierto algunas que me han llamado para preguntar e interesarse por la norma cómo la habíamos hecho y cuáles eran las funciones algunas gobernadas por su propio partido

es anunciar las ayudas a bombo y platillo y luego es que tarden y tarden y llegue alguna orden o no lleguen y luego se publiquen yo por las mañanas cuando llego al despacho casi todos los días pregunto lo primero ha salido alguna orden nueva de las comunidades autónomas monitorizamos

y muchas hemos escuchado anuncios pero no han llevado ninguna orden ni ninguna

tardamos tres días en llevar la orden al consejo de gobierno y se va a publicar la semana que viene esa es nuestra forma de trabajar y luego sobre las cifras

dice usted que los datos están en el informe que no ha justificado ni ha

esos estudios y dónde están yo creo que los responsables públicos

la medida que pasa el sector llevar a la fotocopiadora y repartirla pues mire nosotros lo que hacemos es analizar

esas peticiones del sector desde hace tiempo y las hemos trabajado

que esas cifras no se corresponden con la realidad primero la facturación

otras partes y otros sectores luego los gastos de explotación

diecisiete con una fórmula pues que yo no comparto y que podría ser otra y que hemos discutido y hablamos tranquilamente y trabajamos

todas las medidas que se están tomando por otras administraciones desde el gobierno de españa con una serie de medidas desde este propio gobierno vasco diputaciones ayuntamientos aparte el cálculo y el crecimiento anual

de esa cifra trasladando el dos mil diecisiete hasta ahora no se corresponde con la inflación real bueno pues eso las medidas que vamos

sin cifras o sea sí solo con una cifra pero sin nada que lo respalde detrás y nosotros qué estamos haciendo trabajar con rigor y actuando al día porque las circunstancias son cambiantes que tendrá que haber medidas nuevas

pero obviamente todo gobierno no puede conseguir

la situación del sector de todas sus pérdidas porque son muchos sectores y yo se lo digo y se lo he dicho al sector

desde que he llegado pero también soy jurista y socialista quiero decir

de todo el gobierno que tomamos decisiones que hay que atender a todos los sectores

la salud y la educación vamos a seguir trabajando con el sector por supuesto

cuando presenten presenten con informes reales y con números

y por supuesto con el sector muchas gracias eskerrik asko